buenos días gracias señora presidenta lehendakari consejeros

de la ley puntual para un planteamiento objetivo de presencia en ámbitos extraparlamentarios pero que deciden políticas públicas que deciden ámbitos presupuestarios que pueden decidir

que van ligados a presupuestos públicos así que en ese sentido es una cuestión

objetiva de una ley sería un procedimiento conveniente también y eso es una reflexión que nos lleva la modificación de esta ley un procedimiento

en otros organismos en otros institutos en otras fundaciones o instituciones donde también hay de una manera

para promover un debate de la representación parlamentaria en otras

como no podía ser de otra manera esta es una modificación técnica y de adecuación con un carácter permanente y por ello hemos visto

el criterio del gobierno ha sido un criterio favorable pero un poco receloso al gobierno en su párrafo tercero del criterio emitido en referencia a esta proposición no de ley nos ha llamado la atención también ese recelo

en el tercer párrafo de su criterio en cualquier caso vuelvo a decir es una proposición de ley técnica puntual

en el consejo de administración del instituto de la memoria de la convivencia y los derechos humanos para que estén representados todos los grupos parlamentarios nosotros

discrepancias importantes pero es una ley del parlamento y hay que aplicarla hasta que se modifique y en ese sentido en esos órganos que deciden vuelvo a decir políticas públicas que deciden en base a presupuestos públicos pues tiene que ser compartida por todos los grupos parlamentarios está

no puede estar restringida o limitada como no lo debiera estar en otros organismos que también están por ahí y por ello entendimos conveniente

ahora que se van a poner en marcha otra vez las reuniones del

hay que analizar presupuestos hay que analizar otro tipo de políticas en relación con el fondo y con los trabajos

y votaremos a favor del procedimiento y votaremos a favor de la definitiva ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos zabala andrea zurea da hitza

en la que venían participando todas las fuerzas políticas después del reciente debate sobre la constitución de la ponencia de memoria y convivencia

hoy vamos a abrir las puertas a todos los grupos parlamentarios para participar en los trabajos de gogora

y la recuperamos y aprobamos en la pasada porque gogora nació con esa vocación de participación de todos quienes tenemos que aportar a la construcción de la convivencia y a la memoria desde las políticas que diseña el instituto y en ese todos estamos también aquellos a quienes los ciudadanos nos han otorgado representación parlamentaria

porque solo cuatro de los grupos existentes entonces tenían intención de participar pero hoy sabemos afortunadamente que no hay nadie que se quiera sentir excluido y eso creo que merece esa reforma puntual y concreta los socialistas queremos quedarnos con eso por encima de todo lo demás

con un gran esfuerzo de consenso con mucho esfuerzo entre incluso quienes en el momento original en el dos mil doce manteníamos serias diferencias en otros asuntos nuestro partido entonces gobernaba y consideró que esta tarea era crucial como aún lo es pero también que tan crucial como su construcción es imprescindible el concurso

consenso discreción y seguridad jurídica es lo que nos ha guiado siempre en el recorrido que nos condujo al fin de los asesinatos y es lo que nos ha guiado en la reparación de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos por eso a pesar de las grandes diferencias

y otros en la oposición buscamos un acuerdo que implicara a los nacionalistas cuando cambió el gobierno ambos partidos nos sentimos concernidos por la misma responsabilidad y conseguimos un acuerdo los promotores de la iniciativa asumimos desde el principio

compartida por todos no fue posible y no faltaron críticas no ya duras sino en algunos casos incluso excesivas por parte de quienes votaron en contra y por parte de quienes se pusieron de perfil sin embargo

y a nosotros nos pareció adecuado y conveniente hoy dos años después

que ha mostrado de forma clara su voluntad de ser también agente activo en la construcción de políticas de memoria y convivencia nosotros no queremos que nadie que quiera estar se quede fuera nadie todas las voces son necesarias todas las ideas y aportaciones que se quieran realizar se encaucen en el instituto hace apenas tres semanas debatíamos aquí sobre cómo nos organizábamos nosotros en el mismo parlamento para hacer nuestra tarea pendiente en la ponencia que vamos a constituir no fue posible la unanimidad y lo lamentamos y aun así seguimos queriendo

las voces y las aportaciones de todos los que nos sentamos en estos escaños señor barrio la suya por supuesto también el hecho de que la reforma legal que hoy aprobamos venga promovida también por ustedes la queremos interpretar como un rayo de esperanza para el futuro si ese partido hace dos años dudaba

parece que esas dudas al menos en parte se han disipado y eso ha podido ser posible porque ustedes han estado presentes en el instituto eso es lo que queremos que ocurra también en la ponencia porque los mismo que para el foro parlamentario en la ley de gogora

que se pueda reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de terrorismo violencia o conculcación de derechos humanos ese es el camino con el claro objetivo de ir recomponiendo confianzas en todos los foros que se nos presenten

así lo entendimos en el dos mil ocho cuando hicimos la ley de víctimas del terrorismo a pesar de estar en la oposición a pesar de que ese proyecto llegó cuando aun resonaban

e incluso cuando el resto del debate político estaba marcado por la ley de consultas

nos hizo eludir nuestra responsabilidad en la reparación de las víctimas y también lo entendimos así cuando propugnamos un acuerdo parlamentario que acompañase las políticas de convivencia impulsadas por aquel gobierno socialista a pesar de la oposición en otras materias el pnv también supo entender que había que dar cauce

y a la ley del instituto de la memoria que tuvimos que recuperar en la legislatura siguiente con la misma base de acuerdo y cuando a pesar de nuestras diferencias desde el gobierno anterior

también los socialistas supimos estar a la altura ninguna de esas leyes consiguió el apoyo unánime de la cámara pero todas ellas todas han acabado asentándose
como un espacio compartido por todos por eso queremos que hoy todos puedan participar también en gogora muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

aldaketa honen arrazoi eta helburuak el instituto gogora nació con el objetivo de diseñar gestionar y evaluar las políticas públicas de memoria

instrumento del instrumento diría yo de la administración pública del gobierno vasco para gestionar estas políticas

además de un instituto público para la gestión pretende también pretendía y sigue pretendiendo canalizar la participación y el pluralismo político y estos principios son inspiradores desde el inicio del instituto gogora la voluntad de los impulsores de la ley de creación del instituto de la

ha sido siempre la de la construcción de una memoria plural e inclusiva y

sin embargo después de las elecciones últimas

ha quedado demostrado que quedaba cojo en uno de sus apartados porque no permitía la participación de todos los grupos parlamentarios de todas las sensibilidades políticas de esta cámara y como han dicho

en el uso de la palabra la voluntad de los proponentes la voluntad del legislador ha sido siempre la de la participación plural y la colaboración entre todos hasta ahora en el desarrollo en los años que llevamos

los trabajos los presupuestos los planes de actuación han concitado un amplio consenso en torno a todos los proyectos los debates que se han producido dentro del seno de los órganos de dirección y las acciones que ha puesto en marcha el instituto gogora han concitado no solo el acuerdo sino

una opinión muy favorable muy positiva de todos los partidos políticos de todos los miembros

de las asociaciones memorialistas de las asociaciones de víctimas etcétera por lo tanto

para preservar ese valor viene esta proposición de ley

espíritu de trabajo esta actitud que mantienen todos los integrantes del instituto gogora

organismos que trabajan las políticas de memoria y de convivencia en euskadi

el anterior consejero de hacienda el señor gatzagaetxebarria no se ha producido y algunas de las cuestiones que yo misma adelanté

de las capas más vulnerables de la sociedad sí han llegado izatez astelehenean bertan euskal dirubideen kontseiluaren bileran

y como ya veníamos avisando desde principios de año los datos han sido malos no han cumplido las previsiones de recaudación ni siquiera las revisadas a la baja en octubre cuando ya era más que evidente que aquel siete por ciento de incremento de recaudación sobre cierre de dos mil quince que habían previsto gobierno vasco y diputaciones en el consejo vasco de finanzas no era más que un

quinientos cincuenta millónes menos de recaudación y este dato señorías

no es una excepción es un punto y seguido en una senda de no cumplimiento de previsiones de recaudación

que se ha demostrado del todo insuficiente para el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad del impulso de nuestra economía y del desarrollo de nuestra sociedad

este incumplimiento es un dato más un incumplimiento más

actuales socios de gobierno para contra restar el camino iniciado en aquel momento en gipuzkoa por euskal herria bildu una contrarreforma que nació coja

por una visión parcial y cortoplacista del sistema fiscal una contrarreforma fiscal que ya en dos mil trece advertimos que no iba a responder a las expectativas creadas por sus impulsores y que hoy en dos mil diecisiete

que nos las cumple es la crónica de un fracaso

no es el fallo en la estimación sino las consecuencias que esta tiene para la ciudadanía y con razón

a debatir aquí sobre estas cuestiones en la pasada legislatura usted permaneció

ya que usted entonces ya era plenamente consciente de que esta reforma fiscal

insuficiente una reforma fiscal que ha abocado a los presupuestos públicos a una situación de estancamiento que no contribuye al desarrollo de la sociedad vasca al desarrollo del modelo de bienestar que esta sociedad requiere una reforma fiscal en definitiva que no ha sido capaz

de los mecanismos para responder a los desafíos que nos han impuesto la crisis económica y las erráticas recetas de liberalismo más rancio que se han aplicado contra ella que no ha sido capaz de evitar que nuestra sociedad haya sufrido el envite de la desigualdad

y en definitiva de la merma de derechos sociales a los que nos han llevado

de los diferentes gobiernos aquí en madrid en la troika o la unión europea

que es prioritario aumentar la recaudación porque la evolución actual de los ingresos no permite sostener las políticas de gasto de las administraciones públicas porque ha llegado el momento para un aumento en la presión fiscal y porque el gobierno sí tiene algo que decir sobre política fiscal

el setenta por ciento de lo recaudado pero lamentablemente

a marcar el ritmo y la dirección de la política fiscal en este país en definitiva a corregir al consejero a enmendar al consejero a contraponer una mayor presión fiscal al desarrollo de la economía

efectos perversos en sus resultados empresariales en definitiva el abc del liberalismo de libro que hace ya tiempo que se demostró erróneo y ya hemos visto este lunes también en el consejo vasco de finanzas cómo se ha dado han dado carpetazo al tema una vez más esperar y negar que son rehenes de una política fiscal fracasada

esconder la cabeza para no ver lo evidente para no enfrentarse a lo inevitable por ello

agentes sociales venimos largamente reclamando

necesaria esta reforma fiscal la modificación por ejemplo del impuesto de sociedades poniendo coto a las múltiples deducciones que dejan

los tipos nominales del impuesto ha llegado el momento de abordarla de una vez por todas y por todo ello desde aquí invito al gobierno desde aquí invito al señor lehendakari

a través de la política fiscal le invito a que se bajen de platero

en una política redistributiva de la renta en la que pagan más realmente

recuperando por ejemplo el impuesto sobre la riqueza que ya se instauró en gipuzkoa grabando aquellas empresas que como en güeñes o en muskiz contaminan

menos sana para todos nosotros le invito a que junto a la mayoría política de este país dejen de cortejar y hacer seguidismo de la política económica dictada por confebask y se unan a nuestras demandas es una oferta de diálogo en una época donde la ciudadanía nos invita a realizar acuerdos de país ante el muro conservador que nos asalta

o del adur no se tome a mal la crítica de verdad mire con nosotros hacia delante

no se cumple el dicho de que cualquier tiempo pasado fue mejor eta horregatik gure proposamena gure herriaren garapena ahalbidetzeko

la política fiscal nos afecta a todos y a todas y por ello

a un debate público a un debate público en este caso a través de una comisión especial parlamentaria donde todos los agentes socioeconómicos académicos y políticos podamos plasmar nuestra visión

donde en definitiva acordemos el rumbo a seguir en política fiscal para sostener las políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de nuestra sociedad hemos intentado el acuerdo con todos los grupos enmendantes y agradecemos realmente el acuerdo alcanzado que lo tenéis ya todos sobre la mesa

este acuerdo no ha podido ser más amplio por la negativa de admitir el debate público la creación de esta comisión especial parlamentaria que ya he comentado

porque escudarse en cuestiones competenciales

porque escuchar porque hablar porque debatir porque acordar y porque proponer no puede ser nunca un problema competencial

eta mila esker tejeria andrea la verdad es que

hablar de una reforma fiscal de forma sosegada y constructiva cuando apenas una semana antes de producirse este debate se lanza a los medios de comunicación un globo sonda a cerca de una posible subida de impuestos que posiblemente ya cercena la propia posibilidad del debate sosegado antes incluso

sin embargo desde elkarrekin podemos consideramos que este debate es un debate fundamental para el país porque el bienestar de las personas

equilibrado redistributivo y suficiente por eso consideramos que en este debate hay dos cuestiones fundamentales a plantear la primera es

hacia dónde tiene que ir la reforma porque parece evidente que hay un cierto consenso en que hay que hacer una reforma pero la cuestión estaría en si se hace en un sentido u otro y ahí posiblemente discreparemos respecto del primer punto

yo comenzaría preguntando a los representantes del pnv a cerca de las declaraciones del consejero azpiazu la semana pasada

y cuando lanzó su globo sonda la pasada semana faltó tiempo para que voces de su propio partido que son representantes institucionales desautorizara inmediatamente al consejero antes incluso de que pudiera plantear su reforma con un mínimo rigor y con un

al consejero azpiazu o defienden a las voces de su propio partido que le desautorizaron

porque no estaría mal recordar a esas voces la vigencia en euskadi de una ley del año mil novecientos ochenta y nueve de armonización coordinación

observarán las normas que en materia de armonización fiscal establezcan las leyes del parlamento vasco les pregunto en segundo lugar si el pnv defiende la vigencia de esta ley

se lo pregunto porque pareciera que en este país las reformas fiscales se hacen siempre a espaldas del parlamento en el coto cerrado del consejo vasco de finanzas o en los despachos de algunos partidos

su liderazgo para impulsar este sistema tributario

tan solo por eso ya merecería la pena apoyar la propuesta de creación de una ponencia o de una comisión especial

proponemos en nuestra transacción en segundo lugar respecto del tipo de reforma fiscal que necesita euskadi antes de entrar

que es muy importante para saber por qué estamos en esta situación porque la primera pregunta que tenemos que plantearnos es por qué por qué nuestros territorios tienen ahora mismo este desequilibrio entre ingresos y gastos y a primera vista la solución parece sencilla la respuesta parece sencilla parece que es una cuestión provocada por la crisis efectivamente la crisis ha provocado un descenso en la recaudación fiscal

y ha llevado a las distintas administraciones a tener que recurrir a endeudarse a elevar sus ratios de deuda pública

a los gastos corrientes euskadi es un buen ejemplo de ello porque en el dos mil siete teníamos una deuda de seiscientos millónes de euros y ahora mismo

euskadi ha multiplicado por veinte su deuda pública hasta el punto de que ahora mismo nos corresponde a cada habitante de euskadi

pero la respuesta no es tan simple como mirar solo hacia la crisis

se debe a que en épocas de bonanza fiscal anteriores a dos mil siete los diferentes parlamentos y en euskadi las juntas generales legislaron reformas fiscales dirigidas casi exclusivamente a reducir la tributación de las rentas del capital y de los beneficios empresariales

la posibilidad la capacidad de las arcas públicas de hacer frente a los vaivenes de la economía y nos han traído en última instancia

y así se cumplió la máxima de las políticas neoliberales que dicen que cuando la economía va bien se bajan los impuestos y cuando va mal se bajan también los impuestos

y qué hicimos aquí en euskadi en época de vacas gordas pues lo mismo que el resto bajar los impuestos a quienes más tenían

esta semana ha propuesta el consejero azpiazu bajar rebajado ya en dos mil siete del treinta y tres al treinta por ciento y el tipo máximo del irpf pasó del cuarenta y ocho al cuarenta y cinco por ciento y claro dónde estamos ahora ahora cuando muchas economías incluida la vasca soportan unos ratios de deuda pública astronómicos

ir a la austeridad y el recorte de gasto pero claro si entonces no se hubieran rebajado los impuestos posiblemente la capacidad

y a la crisis sería mucho mayor y nos permitiría endeudarnos sin tener que superar por ello los límites que nos imponen nuestra pertenencia al euro en cualquier caso

asistimos con satisfacción al hecho de que incluso aquellos partidos que durante estos años han asumido la austeridad como su nuevo

ahora asuman por primera vez la necesidad de subir los impuestos porque efectivamente lo que antes no se planteaba ahora ya se tiene en cuenta y es que podemos cuadrar las cuentas públicas

y no solamente rebajando los gastos para equilibrarlos con los ingresos que tenemos así que nunca es tarde si la dicha es buena y por lo menos tenemos la satisfacción desde elkarrekin podemos de que ya no seamos el único grupo que defiende ahora mismo esa nueva vía que hasta ahora no se ha contemplado

nos están avocando a un deterioro social nos están avocando a que cada vez más y más personas sean excluidas del sistema

la solidaridad de nuestra sociedad y en tercer lugar incluso aunque no nos crean la esencia misma de la democracia tal y como los estamos conociendo hasta ahora

la pregunta ineludible es hacia dónde deberíamos orientar una posible reforma fiscal y aquí tenemos seis planteamientos que hacer desde elkarrekin podemos en primer lugar tenemos que decir que una reforma fiscal que merezca tal denominación en ningún caso puede tener como único objetivo

una política fiscal de verdad tiene que ser un potente instrumento de gobernanza que permita por un lado redistribuir la riqueza y por otro lado impulsar un sistema económico más equilibrado y sostenible

si limitamos su alcance a una mera cuestión de ingresos o gastos limitando desde el principio en segundo lugar parece evidente que la suficiencia del sistema tributario pasa prioritariamente por una lucha decidida y coordinada contra el fraude fiscal y quiero hacer hincapié en la palabra coordinada porque a día de hoy las haciendas vascas no solamente no son ejemplo de coordinación sino que a día de hoy son incluso son más opacas que la agencia tributaria estatal que ya es decir

admitimos y consideramos además necesario que además de la lucha contra el fraude fiscal sea necesario incrementar el esfuerzo fiscal pero este incremento no puede ser indiscriminado porque si las reformas anteriores a dos mil siete beneficiaron especialmente a las rentas de capital y a los beneficios empresariales ahora tendrán que ir las reformas dirigidas a revertir aquellos efectos

elevar los impuestos a toda la ciudadanía y en ningún caso deberán recaer sobre las rentas del trabajo que a día de hoy ya soportan el noventa por ciento de la recaudación fiscal del país

de sucesiones y donaciones o para incrementar la recaudación

en cuarto lugar consideramos que a pesar de las limitaciones que tienen las haciendas vascas

no están agotadas las posibilidades de instrumentos como los de fiscalidad medioambiental que no solamente nos permitirían incrementar los ingresos sino que nos permitirían impulsar un sistema económico más moderno equilibrado y sostenible en quinto lugar con ánimo de tranquilizar al señor

desde elkarrekin podemos tampoco consideramos necesario una subida indiscriminada del impuesto sobre sociedades ni de su tipo máximo lo que ahora mismo está lastrando la recaudación del impuesto sobre sociedades

incentivos fiscales y las bonificaciones que se están aplicando a algunas empresas y quiero terminar hablando aquí de las prácticas de elusión fiscal que también en euskadi

y que suponen el setenta y cinco por ciento del fraude fiscal asociado a los beneficios empresariales palabras que quizás no les suenen como operaciones vinculadas de entidades de tenencia de valores extranjeros sicav

son algunas de las vías mediante las cuales ahora mismo las grandes empresas están ejerciendo una competencia desleal e ilegítima

a la reforma fiscal compartimos con los proponentes y eso no creo que sea ninguna novedad que la fiscalidad es un instrumento útil también lo ha dicho

necesaria para construir un proyecto de país que nos haga progresar como sociedad que nos permita contar con servicios públicos que cubran las necesidades de los ciudadanos la fiscalidad es una de las herramientas más importantes para lograr mayor justicia mayor igualdad mayor solidaridad una sociedad justa la fiscalidad sirve precisamente para dotar de recursos suficientes en las administraciones públicas

para redistribuir eficazmente la riqueza entre la población y para impulsar el crecimiento y la creación de empleo esto que yo he dicho ahora lo han dicho en mucho más tiempo la portavoz de eh bildu y el portavoz de podemos es decir en lo básico parece

y nosotros estamos tan convencidos de ello que lo hemos incorporado al acuerdo de gobierno que hemos suscrito con el partido nacionalista porque creemos que es necesario preservar un sistema tributario equitativo progresivo suficiente y que garantice

donde tenga la dificultad de entendimiento entre lo que significa un equilibrio entre ingresos y gastos públicos

porque el debate debe ser sobre qué servicios públicos queremos tener y cómo los queremos pagar y nuestra posición sobre ese asunto sobre cómo hay que pagarlo también es clara queremos que paguen todos y queremos que pague más quien más tiene tampoco me he diferenciado de los que han intervenido antes que yo y esta reflexión también creemos que debe ser permanente

que sea una reflexión permanente no significa que las reformas tengan que ser permanentes que permanentemente tengamos que estar reformando por qué pues porque nuestro sistema fiscal también precisa de una cierta estabilidad

tributario es su capacidad de generar estabilidad y certidumbre no solo en la actividad económica sino también seguridad y confianza en los contribuyentes

la normativa debe irse adaptando y debe de responder con eficacia a los objetivos que les he mencionado y que ustedes lo han hecho antes que yo y eso se logra lógicamente con la actualización de la normativa fiscal

eso lo que se ha trasladado en la última reunión del consejo vasco de finanzas y que por cierto ha dado tanto que hablar esta semana y que no obedece a ninguna improvisación ni a ninguna otra cuestión dado que esto que se ha puesto de manifiesto esta semana ya es una reflexión que se hizo cuando aprobamos la reforma fiscal

y a la que nos comprometimos en el acuerdo de gobernabilidad es decir transcurridos tres años desde su aprobación analizaremos los resultados que se han producido veremos las virtudes y los defectos que han tenido con respecto a los objetivos que habíamos

a las conclusiones que obtengamos se corregirán las disfunciones y es muy probable que en el impuesto de sucesión perdón de sociedades todavía tengamos alguna disfunción que corregir y es a lo que se refirió seguramente

pero no lo sabe solo él lo saben también todos los grupos que participamos no solamente en este parlamento sino en los territorios históricos porque es algo que venimos percibiendo según se nos van dando los datos de recaudación trimestral que por cierto hablan ustedes de opacidad de las haciendas vascas y ciertamente datos

web sino también en la información directa que se nos han ido trasladando a los diferentes grupos no solamente al grupo socialista yo puedo dar fe de que al grupo

también incluso a podemos se les ha trasladado la información de forma previa de todas las causas que han afectado a eso que ustedes llaman errores en la recaudación

conseguido solventar con absolutamente ninguna figura tributaria que hubiéramos tenido porque no controlamos de momento desde estos territorios aunque algunos quisieran ni el precio del petróleo ni las exportaciones de gas ni el precio de la energía en ese sentido lo que tenemos que hacer es traer todas esas conclusiones a este parlamento tener un debate

de cómo lo debatimos a veces acertamos con la ponencia a veces con el pleno monográfico resulta que solamente por la cuestión de forma

en el fondo nos habíamos puesto de acuerdo en cualquier caso acepto el guante que usted nos hecha con respecto a que lo que estamos es para acordar y para llegar a soluciones

la política fiscal y eso lo compartimos con ustedes es un elemento de redistribución de la riqueza por eso solamente habíamos presentado dos puntos en nuestra enmienda primero reconocer por este parlamento que necesitamos preservar un sistema tributario equitativo

que incentivara la actividad económica la innovación el empleo el sostenimiento de políticas sociales y servicios públicos y que se impulse desde la oct la actualización de la normativa fiscal

que este parlamento celebre un pleno monográfico previo a la aprobación de esas modificaciones tributarias que resulten necesarias para que podamos evaluar orientar

a los territorios históricos dos objetivos que como ven ustedes son básicos o parecen básicos y que no parecen muy discordantes

por los que me han precedido pero me da la sensación de que a pesar de que a todos nos suena bien la música cada uno

los socialistas escuchamos la música y la letra con nitidez

no la van a pagar las rentas medias ni las rentas bajas y que la factura de no revisar nuestro sistema fiscal tampoco la van a pagar los ciudadanos en recortes de servicios y de derechos

sino que serán aquellas otras con beneficios que no se reinvierten las que tengan que contribuir de una forma más proporcional a esa factura de la solidaridad que les corresponde

y aquí seguimos teniendo como objetivo prioritario lo tuvimos y lo seguimos teniendo la lucha contra el fraude fiscal y seguimos convencidos de que se pueden obtener mejores resultados

sigue siendo fundamental y a pesar de lo que ha dicho el portavoz de podemos se han hecho muchos avances no hace falta más que ver la evolución de las medidas adoptadas no solamente medidas de interconexión sino también de información y de cruce de datos para saber

queda mucho por hacer y hay mucho que todavía coger

haciendo cosas el compromiso de lucha contra el fraude fiscal tuvo su reflejo en el acuerdo con el partido nacionalista vasco en el año dos mil trece a nadie se le escapa

y sigue teniendo su presencia en el acuerdo del dos mil dieciséis con el desarrollo de planes integrales

con la cuantificación de los objetivos de recaudación por este motivo y el aumento de las actuaciones de control de seguimiento de penalización del fraude y la economía sumergida

que no se inicia hoy muy a pesar de que eh bildu haya traído hoy aquí esta propuesta es una camino que ya iniciamos en el año dos mil trece y que por cierto no debió de ir tan mal

cinco puntos la presión fiscal en los próximos dos ejercicios en su propuesta de ahora nos dice tres puntos en los próximos años algo habrá aumentado para usted rebaje su posición es decir no iría tan desencaminada

criticarla cuando usted en sus propuestas reduce esa necesidad no sé si es porque cree que

no hace falta tener esos dos puntos adicionales de presión fiscal no si usted me lo explicará porque tiene un turno para poder hacerlo y así yo también poderla entender

comenzamos una vía en el año dos mil trece en la del impuesto de sociedad para intentar que las grandes corporaciones con sedes en nuestros territorios

no tengan una tasa real del cero por ciento comenzamos una vía ya se lo explicamos para simplificar deducciones desgravaciones y exenciones es un extenso laberinto en el que común de los ciudadanos y pequeñas empresas se pierden pero que algunos saben utilizar

ahora tocará el análisis de si esos objetivos que se pretendieron con esta figura tributaria han cumplido las expectativas y si no es así saber cuáles han sido los defectos e intentar corregirlos pero será a la vista

dónde se está produciendo y qué es lo que hay que modificar cuando se pueda realizar y no antes y esta es una pregunta que

con letra fina pero sí lo hacemos en los territorios históricos en los que yo he estado bastante tiempo y le pude preguntar a la portavoz de eh bildu que llevaba los temas de asuntos económicos

proponerme las modificaciones del impuesto de sociedades para corregir las disfunciones y la contestación fue clara y nítida no no sé exactamente qué es lo que está fallando intuyo

no hay que intuir hay que saber esperemos modifiquemos y acordemos

hobekuntza prozesuetan una reforma que nació coja esatea

deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible la conversación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía

debate novedoso que tenemos hoy en este parlamento y

hace unos años nosotros sí entramos entramos para rebajar la subida de impuestos que se planteaba en algunos casos para que los que menos ganaban no pagaran más

señora pinedo fallo en la estimación de ingresos no es cierto

no ha habido un fallo no ha habido un fallo porque fallo

hacemos una estimación de ingresos pero claro cuando

sube es superior a la prevista y resulta que la recaudación de ingresos es inferior en más de la mitad

eso no es un fallo eso es que expresamente

pero daba muy bien para traer presupuestos aquí y en todas partes

y luego en la ejecución del presupuesto pues vamos haciendo lo que llamaban inejecuciones y haciendo los recortes especialmente en lo que eran las inversiones

por lo menos en los dos grupos de podemos y de bildu se felicitan de que el señor azpiazu

no es verdad que el gasto corriente del gobierno vasco haya disminuido si usted mira los datos del dos mil quince que es el último que tenemos de cierre porque el del dos mil dieciséis tendremos que esperar al dos mil diecisiete para saberlo

usted verá que es el año en el que el gobierno vasco más gasto corriente ha tenido y sin embargo verá como usted decía porque usted decía

se bajaron los impuestos yo le voy a dar un poco la vuelta a su frase fíjese según usted cuando los impuestos eran más bajos recaudábamos mucho más y luego hemos subido los impuestos y todavía no recaudamos lo que recaudábamos cuando eran más bajos

a lo mejor hay que bajar los impuestos para que se cree más empleo

y recaudemos más es una posibilidad yo le digo solo que se la planteé con su discurso con el que usted nos ha traído hoy aquí que en parte estoy de acuerdo con lo que usted nos ha dicho y la clave

que no es verdad que no es verdad la clave está en la eficiencia y en la eficacia del gasto

cómo este gobierno es el que más gasta en educación y es verdad pero no tenemos la mejor educación

hasta en la televisión pública y es verdad pero no tenemos la mejor televisión pública ni mucho menos es más no la ve casi nadie con lo cual alguien tendría que hacérselo mirar un poco

más de cien millónes en euskera sociedades y entes no se ha cerrado ni uno

altos cargos tenemos cada vez más y de la eficacia y eficiencia de la gestión de la rgi

no hace falta más dinero hace falta gestionar mejor pero mucho mejor que se puede hacer y es bastante sencillo y fácil

al señor becerra nos hablaba de las sicav no se preocupe aquí no queda ni una en el país vasco no hay sicav estos señores dijeron

pagan menos impuestos así que vamos a grabar las sicav y entonces qué ocurrió que se fueron todas

cero en el país vasco cero y eso qué supone

los ricos van a pagar más resulta que se van y nos toca pagar más a los demás y en este caso es a la clase media

y a los funcionarios esa es la realidad y todo lo demás son palabras que quedarán muy bien

y como se me está acabando el tiempo al partido socialista y al gobierno vasco les tengo que decir una cosa al partido socialista

no no entonces me voy a limitar a leerles porque aquí algunos deberían de leer lo que dice el concierto económico

artículo uno las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener establecer y regular dentro de su territorio su régimen tributario

no es aquí verdad digo no desarrollan nada verdad digo que sabemos de qué hablamos todos y cuando el gobierno vasco y el partido socialista nos presenta una enmienda transaccional

nosotros trajimos la ley para favorecer la creación del autoempleo y de los emprendedores

en el órgano de coordinación tributaria las medidas fiscales para favorecer eso y estos dos señores lo recurrieron

porque supuestamente nos extralimitábamos nos extralimitábamos en eso pero ya lo más patético es el punto segundo

con anterioridad a la aprobación por parte de las instituciones competentes supongo que las juntas generales de cualquier modificación fiscal de esos que dice el concierto económico que tienen la capacidad el parlamento vasco celebrará un pleno monográfico

fiscales aprueban los territorios al año se lo han planteado el señor consejero habla con los diputados forales de hacienda

si yo me leo el artículo dos del concierto económico que habla de los principios generales

tendremos que colegir que entonces tendremos que hacer otro pleno monográfico en el congreso de los diputados para ver si las diputaciones forales antes de aprobar nada

o más la misma esto es lo que ustedes han traído hoy aquí en principio

porque claro si una diputación presenta una norma foral por cierto se están tramitando ahora la modificación de la norma foral tributaria la adaptación

no les veo a ustedes pidiendo la paralización y vamos a hacer aquí un debate monográfico para ver qué opinamos de esas leyes

no les he visto hacerlo se están tramitando ahora las tres juntas generales están tramitando al menos

modificaciones fiscales en este momento por lo tanto esto que nos han traído aquí qué es bueno yo supongo qué es que es parte de la iniciativa de aquellos lo que no puedo entender es que ustedes

y yo por último voy a hacer una reflexión porque claro cuando aquí se habla de hay que subir la presión fiscal que es la iniciativa que nos traen ustedes para qué es la presión fiscal cómo se mide la presión fiscal

recaudación tributaria entre pib de qué depende que suba o baje

claro del pib y por qué no hablamos de esfuerzo fiscal

el porcentaje del sueldo que dedican los ciudadanos a pagar impuestos y resulta que en españa están en el cuarenta por ciento el más alto de

por qué no nos fijamos en los ciudadanos en los contribuyentes lo que pagan en vez de estar ustedes todo el día pensando en vamos a cobrarles más para gastárnoslo en esas cosas que no nos interesan por lo menos a nosotros no nos interesan para nada para nada

que hacen un esfuerzo fiscal de los más altos de europa porque se gestiona mal desde las administraciones vascas luego continuaremos señora presidenta

sustanciales y llamativas en política fiscal

nos ha hecho el abc suyo otra vez como yo hago el mío pero claro exprimir a los ciudadanos y todas estas cuestiones

que vaya orientado a eso yo tengo muy claro y desde eh bildu tenemos muy claro quiénes no están pagando lo que deben no somos nosotros los que pusimos

múltiples deducciones en el impuesto de sociedades que no nos llevan a ningún sitio productivo y ni siquiera somos nosotros los que seguimos teniendo por ahí vacaciones fiscales que se hicieron en su momento u otras cuestiones pero vamos el debate

señor damborenea no era exactamente lo que ha venido usted a contarme hoy aquí castelo andrea eta gorospe andrea azkenean

elkarrekin aurkeztu duzuelako que se necesita estabilidad y certidumbre es algo que siempre venimos oyendo

en solfa eso eso es evidente pero insisto que esta contrarreforma fiscal era evidente que no iba a dar

todos sabemos que existen disfunciones a corregir especialmente en el impuesto de sociedades

en el debate del dos mil trece yo misma se lo dije a su compañero que en aquel momento llevaba las cuestiones de política fiscal le dije nos encontraremos no tardando mucho asumiendo

de grietas lleno de agujeros y que tiene más deducciones más bonificaciones y todo lo que uno le quede inventar que te puedes imaginar

esos son las empresas grandes que las saben utilizar y demás claro pero es que son ustedes

aunque se les avisó que aquel impuesto necesitaba adelgazar

y todo lo que han venido ustedes aquí a decir es una enmienda a la totalidad a todo lo que dijo el señor azpiazu la semana pasada a todo absolutamente a todo

no hacen absolutamente nada de lo que él dijo la semana pasada ni siquiera lo respaldan me parece absolutamente normal que no haya venido el señor azpiazu

pero la realidad es que el impuesto de sociedades después de la reforma sigue recaudando menos que hace ocho o nueve años cuando las empresas ya están dando otros beneficios por lo tanto ahí no hay

es verdad que se acordó que hay que acordar lo de las eskumenak eskumenak gora eta eskumenak behera

no hubo debate posterior porque no abrieron el debate ustedes acordaron ustedes hicieron punto y pelota y en el acuerdo de

tienen el comodín del público con algunos territorios se dice bien claro

en el primer semestre del año se deberá abordar el debate fiscal con agentes económicos y sociales

y eso es lo que nosotras también proponíamos aquí un debate abierto vamos a escuchar a todo aquel que tiene algo que decir en este país sobre política fiscal vamos a abrir las puertas de este parlamento porque

el reflejo de los tres territorios es este parlamento el que llega a los tres territorios no nos hagamos trampas al solitario me dejas una dejada al txoko la señora gorospe de que eh bildu tiene muchas voces tela que me lo diga usted esta semana

absolutamente en la soledad más absoluta al señor consejero que me diga el pnv que me venga el pnv a hablar de voces discordantes tela

aquí a lo que hemos venido nosotros lo que proponíamos al final

pactar una hoja de ruta porque sabemos que en política fiscal tenemos puntos distintos y evidentemente nosotros proponemos

y la política fiscal evidente y eso nadie lo va a negar pero proponíamos

para hacer un debate público para escuchar una hoja de ruta como en la rgi o como en lanbide se ha pactado en este parlamento

y se ha hecho en este parlamento y por qué no en la política fiscal que nos influye a todos y a todas

señora gorospe estamos haciendo tan sosegado el debate

a ver si en esta ocasión apoyan ustedes al consejero azpiazu o apoyan a las voces que han contradecido

defienden ustedes la aplicación y la vigencia del ley de armonización

a la representante del partido socialista y al representante del partido popular defienden ustedes la competencia de esta cámara para ejercer la armonización fiscal

son los sempiternos defensores de la ley defienden ustedes una ley vigente eso es lo que tienen que responder en segundo lugar ya

hacerse una tercera pregunta y es por qué la institución que gasta el setenta por ciento tiene el setenta por ciento del gasto de este país está atada de pies y manos precisamente para ejercer

a sus necesidades presupuestarias porque aquí no venimos solamente a hacer debates que conciten el apoyo político como ha dicho la señora gorospe

para sordos yo le preguntaría a la representante del partido socialista en la reforma que se está planteando qué papel tiene ustedes dónde tienen ustedes voz por qué

porque es ahí donde se va a decidir esta próxima reforma fiscal ustedes deberían ser los más interesados en que y las más interesadas en que en esta cámara hubiera

que el que se pueda dar en un pleno en una comisión en una ponencia ahí es donde se sustancia realmente la opinión de las personas expertas y demás y realmente están ustedes defendiendo una postura

porque si nos estamos escudando en problemas competenciales en problemas competenciales que parece ser

lo que estamos olvidando es de los problemas de las personas y de las

décimos defender porque ahora mismo un sistema fiscal que no garantice el bienestar de las personas y que no garantice el desarrollo equilibrado de la economía evidentemente no está dando respuesta de sus problemas

ni deducciones ni exenciones revisarlas porque hay que ver cuáles son cuáles son equitativas cuáles no lo son

al impuesto de sociedades cuáles no están ayudando y evidentemente vuelvo a reiterar que aquí tenemos que hablar de la elusión fiscal

bueno es posible que no existan pero hay otros muchos instrumentos que ahora mismo hay otros muchos instrumentos que ahora mismo están haciendo

se vean sometidas a una competencia desleal e ilegítima por parte de multinacionales que están pagando sus impuestos en luxemburgo está usted de acuerdo con que eso sea así

porque ustedes dicen defender a los empresarios a las empresas pero el problema que tenemos aquí es que hay multinacionales que no están pagando los impuestos aquí y sin embargo están haciendo competencia a las empresas que sí los pagan por lo tanto el problema de la elusión fiscal no se reduce a que la sicav esté aquí o en madrid es un problema mucho más grave de lo que usted da a entender

al decir señora castelo que no hacemos nada en fraude fiscal se está haciendo

insuficiente y descoordinado y yo he hablado de la coordinación como asunto fundamental evidentemente supongo que ustedes tendrán alguna capacidad para hacer valer el pacto de gobierno que han firmado y espero que sea así

muy importante en el cual se están dando pasos pero las haciendas están dando pasos

cuando se han visto ahogadas cuando ya no han tenido otro remedio hasta entonces la lucha contra el fraude fiscal ha sido una cuestión secundaria en las haciendas vascas y bueno por último tampoco estoy de acuerdo con la afirmación del señor damborenea digamos desde elkarrekin podemos

que la ciudadanía tiene que pagar más no si lo primero que hemos dicho es que las reformas fiscales que se hicieron fue a las rentas más altas y sin embargo a las rentas medias y bajas es a las que se ha cargado toda la fiscalidad

aquellas que se beneficiaron de las anteriores reformas fiscales que son las rentas más alta a las que por cierto

debate sosegado sosegado sí pero con pasión porque cuando tienes pasión es porque el tema

es importante y además necesario tomarlo con mucho impulso y con mucho

la propuesta que hemos presentado el partido socialista y el partido nacionalista y usted me lee las partes de la legislación que quiere

y lo que hemos dicho y además tenemos muy claro las competencias y usted también las tiene sabe perfectamente lo que puede hacer este parlamento que puede armonizar en política fiscal para que

sean tratados de igual forma y reciban de igual forma porque ese también es nuestro modelo me imagino que será el suyo que no irá a los reinos de taifas

puntillosa a la hora de hablar aquí lo que hablaba es que donde se hace la aprobación de las normas lógicamente

fiscal entendemos cualquier modificación fiscal que afecte a las figuras tributarias por modificación no por adaptación de normativas pero bueno

a aquella reforma que se proponía no compartía usted el modelo hablaba que era mejor que los ciudadanos fueran libres y que tendrían más dinero y que fueran ellos los que

pero eso son las cosas que pasan cuando se habla en esta tribuna y en otras

en este momento no se quiere apoyar que sea un pleno monográfico donde debatamos del tema de fiscalidad porque hace tres años nos valió

el debate público por tres veces lo tuvimos que traer en la anterior legislatura por tres veces pero no perdimos el empeño la primera no nos hicieron caso la segunda tampoco y la tercera como suele decir el refrán a la tercera va la vencida

queremos seguir debatiendo y no es cierto que porque no haya una ponencia no vayamos a tener

solo dos muy diferentes una la que hace lab sobre política fiscal y modelo tributario

y expertos que hablan del tema del modelo fiscal también es decir no es necesaria esa ponencia sí es necesario un debate en el que acordemos

base posible las medidas tributarias que tienen que ser posteriormente aprobadas en las juntas generales pero a mí me da la sensación que esto es un poco pues eso usted ha dicho un debate para sordos

a algunas preguntas tampoco a mí me han respondido a otros quiero decir yo he preguntado por qué ahora la presión fiscal puede ser menos que hace tres años si es que eso significa que la reforma fiscal fue en buena línea

tampoco se me ha contestado bueno al final aquí la tribuna la utilizamos para la que lo utilizamos

es decir cuando una ley no gusta se debe de pelear para cambiarla desde los instrumentos que tenemos pero mientras no conseguimos la mayoría suficiente para cambiarla la tenemos que respetar

las reglas del juego democrático y nosotros ahí somos unos firmes convencidos

por tanto nos queda un camino que recorrer porque tenemos un semestre para analizar y evaluar yo he dicho que somos conocedores o que intuimos por los resultados en recaudación que ha tenido el impuesto de sociedades que los objetivos que nos propusimos

puede que no todo sea como ustedes dicen esa maraña de deducciones y bonificaciones porque ya se recortó

esas bonificaciones y deducciones y quedaron solamente algunas no todas y también hubo un tipo efectivo que tiene que hacerse cumplir y hay que saber si eso está funcionando y si no funciona por qué

y cuando tengamos esos datos es cuando podremos también acertar en el tipo de reforma que tenemos que realizar para no perjudicar a aquellas empresas que reinvierten correctamente sus beneficios en cuestiones que aumentan la productividad la innovación el desarrollo el medioambiente la protección del medioambiente y acertar con aquellas

de ingeniería fiscal para no pagar lo que les corresponde eskerrik asko

con tanto papel se me ha traspapelado en el que anotaba otra vez

y voy a empezar por respondérselas señor becerra primera cuestión apoya usted

voces sí nosotros apoyamos todas las declaraciones y todas las reflexiones que todos los portavoces y responsables institucionales

cada uno da su versión y su opinión sobre lo que se le está preguntando

tienen un punto de encuentro un punto en común todos ellos y dicen déjennos analizar los datos déjennos evaluar los resultados de esa reforma fiscal

hacerles propuestas que vamos a compartir entre nosotros dennos ese tiempo para poder hacer ese ejercicio segunda pregunta creo recordar

la ley de armonización aprobada por este parlamento respuesta sí por eso nosotros en nuestra iniciativa planteábamos y como grupo parlamentario en todas nuestras propuestas planteamos que se trabaje de forma armonizada que el debate reflexión y la aprobación de las normas forales que correspondan

porque ese es el modelo de país y esa es la estructura y arquitectura institucional que nosotros como grupo político

que usted puede no compartir puede presentar otro modelo usted se presenta a las elecciones y depende del resultado electoral que obtenga tendrá más o menos opciones

nos presentamos pero evidentemente la armonización es necesaria por eso le planteamos que en el gobierno el órgano de coordinación tributaria un órgano que tiene la facultad de hacer un análisis de todas las normas forales que se vayan aprobando en cada momento en los territorios históricos

de esas normas y valores y efectivamente se da o no se dan supuestos de desarmonización y en su caso si eso nosotros tendríamos que actuar por tanto creo haberle respondido a las dos respuestas

quiero responderle que quiero decirle a una reflexión que hacía en su primer turno también que en absoluto en absoluto

en el análisis que hace de las haciendas vascas el trabajo de coordinación y de trabajo en común entre ellas y con otros organismos de otra naturaleza en el intercambio de información y de datos para poder realmente hacer su trabajo

y funciona bien y siempre se tiene que mejorar pero como en todo como antes hemos dicho por eso es necesaria la evaluación señor

bueno me quedan dos minutos no hay error en las previsiones mire yo en un debate

la diputada de hacienda foral expresa su total confianza en la capacidad y el rigor del personal técnico en su departamento y señala que han sido los técnicos competentes

elaborado las estimaciones de recaudación tributaria así es y vuelvo a decir

y no creo que nadie vaya a ningún sitio con voluntad de mentir eso es lo que defendemos nosotros y seguiremos defendiendo independientemente de quién esté no hace falta subir los impuestos sino gestionar mejor señor damborenea rigor y responsabilidad o sea son las claves

no tiene usted más que comparar los resultados de endeudamiento de déficit y de los resultados que están y también el grado de satisfacción de la sociedad vasca

de las políticas públicas de las administraciones que están gestionadas en este caso

y por otras administraciones guíese usted por eso

que se hablará con los agentes socioeconómicos inon bez si usted dice que el acuerdo entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco

en materia de fiscalidad qué quiere decir que este acuerdo que hemos firmado con ustedes donde no se refiere al debate público también ha sustraído ese debate público porque aquí lo que dice es que lo que se acuerde se consultará con ustedes con eh bildu con nadie más

defendemos la armonización sí que no es uniformidad porque si no que el congreso de los diputados apruebe todas las normas y se acabó la historia ahora quizás usted no sepa cómo se armonizan los impuestos

aprobada por este parlamento entonces claro no claro claro es que la armonización no se hace en este debate ni en un pleno monográfico

aquí los representantes del partido nacionalista vasco y del partido socialista ahí no se armoniza nada verdad entonces por supuesto que defendemos la ley

porque cada vez que ha venido aquí alguien a decir hay que subir los impuestos a los ricos terminamos pagando los que no somos ricos y le he puesto el ejemplo de las sicav que pagan cero

nosotros los que no somos ricos entonces le reitero que cada vez que alguien como usted viene aquí y dice hay que subir los impuestos a los ricos nos lo suben a los de siempre y básicamente a la clase media y a los que menos ingresos tienen sabe por qué porque incluso si se hacen retenciones aunque no tendrían la obligación de declarar y como no declaran no recuperan la retención

siempre el de las rentas más bajas digo lo tengamos un poco claro señora castelo modelo de ciudadanos libres sí lo seguimos manteniendo y lo seguimos defendiendo y nos parece una barbaridad que el cuarenta por ciento de sus ingresos sea para pagar impuestos porque eso dificulta el ser ciudadanos libres lo entendemos así y señora gorospe

yo entiendo que usted confíe en los políticos del pnv hasta ahí podíamos llegar

en el órgano de coordinación tributaria yo eso no se lo pongo en duda pero claro usted permítame que yo no me fíe tanto de ellos verdad es más me fío más bien poco

políticas progresistas y las declaraciones del señor azpiazu

yo estoy de acuerdo con el señor azpiazu que es una barbaridad que las empresas vascas

que es de los más altos de toda europa que en españa está en el veinticinco y que hay que bajarlo y espero que lo haga y espero que lo haga y nosotros estamos de acuerdo con el señor azpiazu que las grandes empresas tienen que pagar más

con lo cual deduzco que el señor azpiazu está de acuerdo con el señor cristóbal montoro cuando hizo estas declaraciones hace diez días porque claro es que el tipo efectivo de esas grandes empresas que se estaba pagando la legislatura pasada era del tres por ciento

más por lo tanto nos parece muy bien que todos ustedes estén de acuerdo con esto y espero que todos voten

o qué van a hacer claro qué van a hacer incluido el partido nacionalista vasco o tengo que recordarles

no tributan por el impuesto de sociedades que se aprueba en las juntas generales

estatal o tengo que leerles también otro artículo del concierto económico o no sabemos cómo funciona aquí nada y venimos a engañar al personal y nos hacemos trampas en el solitario de verdad quieren que esas grandes empresas paguen más impuestos apoyen al señor cristóbal montoro muchas gracias

igual esaldi honekin tronpatu egiten naizela no teníamos ninguna duda de que

sobre el tema de las privatizaciones de los servicios públicos en esta cámara y en esta legislatura y

pues veíamos conveniente debatirlo en uno de los primeros plenos ordinarios en el fondo se trata de un problema muy profundo se trata de un problema de un mundo privatizable

que no se lo puede permitir tradicionalmente las privatizaciones se vendían como procesos ejemplares loando una supuesta eficiencia del sector privado y apelando a falsos paradigmas de desarrollo y modernidad

sin embargo esto ha cambiado drásticamente radicalmente cuando se ha adoptado una perspectiva

la mayor parte de la ciudadanía valora negativamente estos procesos claro es ahora cuando una mayor parte de la ciudadanía está padeciendo estos procesos las privatizaciones se han convertido en una de las principales políticas económicas aplicadas desde las últimas décadas del siglo veinte

o como un elemento fundamental del modelo capitalista neoliberal impulsado por instituciones como el fondo monetario internacional

o la propia unión europea hoy los servicios públicos

de una ciudadanía que está cabreada por los recortes

de sus condiciones de trabajo o por el deterioro de estos mismos servicios públicos y como verdaderamente coincidimos con esa ciudadanía crítica con las privatizaciones y porque nos preocupa el tema hemos intentado llegar a acuerdo con los partidos de esta cámara hablando con todos ellos

hemos transaccionado una enmienda con el grupo parlamentario

el primer punto acordado pide ni más ni menos que se cumpla la legislación vigente

cumplir la ley pero qué triste es cuando alguien tiene que pedir en un parlamento que se cumpla la ley

y cito textualmente que el gobierno vasco respete y cumpla lo dispuesto sobre externalizacion de servicios en el decreto ochenta y tres barra dos mil diez así como los acuerdos reguladores de los distintos ámbitos de la administración derivados de dicho acuerdo sinceramente no entendería

se nieguen a votar a favor de este punto otra cosa será

se cumpla y muchas veces la derecha ha achacado la insistencia de mantener los servicios públicos fuera de las privatizaciones

pero no nos engañemos esta misma semana el lunes en la comisión de salud hubo una comparecencia de los sindicatos donde

dejaron claras dos cosas fundamentales la primera

es que el decreto ochenta y tres barra dos mil diez no se cumple

lo dijeron claramente los sindicatos no es algo que me esté inventando yo ahora mismo hoy aquí

y nos gustaría que ustedes se comprometieran a cumplir la legislación vigente

entre todos los sindicatos fue que la privatización se materializa indudablemente en una mayor precariedad laboral

que ni puede ni quiere permitirse acceder a una educación privada a una sanidad privada o a otros servicios públicos privatizados

deteriorados o directamente no prestados en ese sentido

de que mientras las administraciones públicas que aplican políticas neoliberales aseguran que la privatización les permite ser más eficaces

que estas externalizaciones vienen acompañadas de rebajas salariales y de un empeoramiento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras para resumirlo en una frase

la privatización de los sectores públicos es ineficiente

y de estudios sin embargo ayer mismo ustedes del partido nacionalista vasco del partido socialista y del partido popular votaron a favor del ceta un tratado de libre comercio

aún más estos procesos de privatización de los servicios públicos en dos mil diez por poner un ejemplo

un informe en el que además de demostrar las ineficiencias de las privatizaciones de estos servicios públicos se podía constatar claramente cómo

afirmaba el mismo que la subcontratación permite pagar salarios muchos más bajos del que le correspondería a un trabajador de esa empresa y además sin ningún tipo de sujeción al convenio correspondiente a esa compañía y es grave

normalizar este tipo de prácticas acaba normalizando la precariedad laboral y es algo injustificable que eso lo haga una institución pública

con el fin de aclarar la situación de contratación de los servicios desde la fecha de entrada en vigor del decreto ochenta y tres barra dos mil diez

hasta la actualidad un estudio que se realice en el plazo de tres meses

mínimo los siguientes cuatro puntos principales el primero debe ser que cifre e identifique la totalidad de los servicios externalizados en segundo lugar debería

y desagregar sus costes tanto los recogidos en el pliego de condiciones como los que finalmente son certificados y liquidados en tercer lugar deberá analizar las condiciones de empleo

número de empleo en cada servicio desagregado por sexo niveles salariales mínimos y máximos de los trabajadores

y convenios colectivos de referencia y finalmente el estudio debería señalar también el proceso que habría que seguir para reintegrar

en la gestión pública y la diferencia económica que habría en comparación con la gestión anterior hagamos un estudio sobre el que poder trabajar y así

podremos ver cuál es la mejor opción para dotar de los mejores servicios públicos a la ciudadanía será la forma de conocer si efectivamente como defiende

de la privatización la externalización de los servicios ha sido positiva

y sobre todo si ha sido positiva para trabajadoras y para la ciudadanía aprobábamos aquí el jueves pasado por unanimidad

una proposición no de ley con vistas a dignificar de una vez por todas las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias para mayores

que para nosotros y nosotras no es comprensible no podemos comprender no podemos llegar a entender una sociedad que ponga la salud y el bienestar de sus ciudadanos en manos de un servicio basado

decíamos entonces y repetimos hoy también que desde elkarrekin podemos no podemos tolerar que los servicios se presten fijándose únicamente en el beneficio empresarial lo que sin duda se traduce en unas pésimas condiciones laborales y en un peor servicio

y no hagan oídos sordos a esos trabajadores y a esas trabajadoras precarizadas

de calidad en los servicios públicos y espero

se dignen a apoyar la realización de este estudio la realización de esta fotografía de nuestra realidad presente para que así

una imagen verídica de los servicios públicos de nuestro país y poder ejecutar un diagnóstico con sendos pilares decía

el actual vicepresidente del comité asesor del consejo de derechos humanos de naciones unidas que toda resistencia a la privatización de los servicios públicos es anatematizada quien quiera que ponga en peligro la riqueza excepcional de los ricos se coloca ipso facto fuera del mundo civilizado la ideología neoliberal

a mí personalmente no me importa colocarme ipso facto fuera del mundo que se hace llamar

si eso significa defender los derechos de la ciudadanía y de las trabajadoras hoy estamos hablando de privatización

de cuestiones de gestión de lo público estamos debatiendo sobre el derecho de la ciudadanía a unos servicios gratuitos universales
y de calidad para todas las personas unos servicios públicos que sean el orgullo de nuestro país eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días a todos

cuando la señora presidenta le ha dado la palabra a usted nos ha dicho que nos iba a hablar de la reducción de las subcontrataciones en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco de las administraciones públicas vascas

y no ha hablado ni una sola palabra de subcontrataciones no ha hablado ni una sola palabra de contratación de las administraciones públicas

que es un concepto diferente por eso le digo que no me deja usted

la globalización hace que las empresas traten de bajar sus costes y eso incide negativamente en las condiciones o merma las condiciones de los trabajares eso no es del todo cierto es decir que yo sepa desde que la empresa es empresa y el trabajo es trabajo aquí se ha tratado de

reducir todo lo posible los costes para aumentar los beneficios bien sean los beneficios económicos

por culpa de la globalización las condiciones de las subcontratas dice usted

absolutamente penalizadas y que han mermado y que han ido hacía atrás para eso qué es lo que propone usted dice vamos a instar al gobierno a que reduzca en todo lo posible las subcontratas de la administración y además vamos a exigirle que las limite a un solo nivel de subcontratación yo me voy al diccionario y digo qué es una subcontrata y en el caso de la administración pública pues mire la administración pública saca un contrato que no tiene que ser un servicio propio

distinto de las que son sus competencias habituales saca un contrato y se lo adjudica a un señor a una empresa esa empresa puede decidir hacerlo por sus medios propios o contratar con terceros ahí es donde se produce la subcontrata de esto no nos ha hablado en absoluto

y entonces viene usted y nos dice que esas subcontratas desaparezcan yo no estoy de acuerdo pero le compro la idea qué ocurriría si esas subcontratas desaparecen

de la administración pública del gobierno vasco de las diputaciones de todos los ayuntamientos porque usted se refiere a todas las administraciones de la comunidad autónoma vasca

esos grandes contratos o los más importante solamente los van a poder realizar

o las multinacionales me sorprende que usted nos proponga eso le digo yo por qué porque las pequeñas empresas los autónomos

porque usted no quiere las subcontratación y hay que reducirla a la mínima expresión

las administraciones públicas sacan contratos qué tipo de contratos y que se puede producir la subcontratación eso está recogido en el texto refundido de la ley de los contratos del sector público nosotros somos incompetentes no se me ofenda

o habilidad para hacer las cosas esa incompetencia nos dice que debiera llevar usted esta propuesta al congreso de los diputados y a la luz y con la influencia que tiene toda la normativa europea

con esa prohibición de subcontrataciones le insisto todos los grandes contratos se los van a llevar las multinacionales que como le ha recordado el señor becerra a su compañero anteriormente

porque ellos no tributan aquí en segundo lugar pérdida de miles y miles de puestos de trabajo de autónomos y pequeñas empresas o empresas locales que trabajan para las administraciones y que ya no van a poder trabajar porque carecen de los requisitos necesarios para optar a esos

con lo cual yo señor bollain no le compro en absoluto la idea porque lo que usted me está proponiendo es cargarse los derechos de los trabajadores

si vamos a perder recaudación si tenemos menos recaudación tenemos menos disponible para dar un servicio a los ciudadanos ciudadanos que van a necesitar más de la administración pública porque se han quedado sin trabajo gracias a la idea fantástica que ha tenido usted

que son los autónomos y las pymes se queden sin trabajo y que no puedan trabajar para las administraciones públicas señor bollain eso es lo que usted nos ha dicho en el texto pero sube a la tribuna nos ha hablado de todo

privatización de los servicios mejorar la calidad e incluso nos ha hablado del tratado ceta pero es que no ha dicho en ningún momento la palabra subcontratación

del ámbito de la subcontratación qué tipo de contratos quiénes dónde se ha ido a la enmienda que le ha presentado bildu

se come toda su posición inicial y habla exclusivamente de un decreto el ochenta y tres barra dos mil diez

residualmente un puntito del artículo sesenta residualmente

ese decreto el ochenta y tres barra dos mil diez que usted ha aplaudido y ha colocado como primer punto

porque estaremos conformes con que se cumpla la ley hombre por supuesto usted no usted no nosotros sí nosotros claro que le exigimos y le pedimos

por supuesto que sí pero no con el objetivo que ustedes buscan que es eliminar todo de externalización de los servicios de la administración qué significa eso construir un modelo enorme de una administración pública muy fuerte que lo haga todo por sí es decir vamos a dejar de lado a las empresas que trabajan para la administración todos a trabajar a la administración que hay paro contratemos a todos los parados hagámoslo todos nosotros

bastante defensores de la libertad de mercado y de la libertad de los ciudadanos entonces ese modelo no cuaja con lo que usted nos está

precisamente no vamos a apoyar la iniciativa que nos ha traído hoy aquí

el objetivo que ha pretendido usted que es dejar sin trabajo a nuestros autónomos a nuestras pymes y dejar a nuestras haciendas forales sin capacidad de recaudación gracias a que lo que hay que hacer es evitar la subcontratas mire usted

sencillamente que hay que mirar mejor las cosas y antes de hacer una soflama que queda muy bien que queda muy bonita quizá para un programa electoral

lo que tenemos que ver es qué efectos puede tener eso en los ciudadanos

eliminar esas subcontrataciones a las que ya nos ha referido porque parece que

pero que sí están en el texto inicial y en el título de la pnl que estamos debatiendo

pobreza y paro para los ciudadanos y para las administraciones públicas respecto de ese decreto del dos mil diez lo apoyamos el cumplimiento claro que sí yo al señor erkoreka que está aquí presente le he pedido en varias ocasiones

que haga por ejemplo cumpla la parte de los deberes sociales a los que se refiere

itzarri en este caso que está recogido en ese decreto que cumplan y que hagan las aportaciones a mí me encantaría que lo hiciera se lo pedí la legislatura pasada sin éxito se lo volveré a pedir esta

en los presupuestos que ojalá me equivoque y ahí aparezca pero es que ese decreto toca muchísimas cuestiones a la que hoy nos toca la privatización la externalización o la subcontratas el artículo sesenta

de una comisión que tiene que hacer unos informes periódicos tiene que ver qué se ha externalizado qué se ha privatizado con qué costes quiénes son esas personas lo han hecho pues eso es lo que habrá que exigir en concreto en concreto no podemos venir aquí con una pnl

si ustedes cierran un poco más el asunto modifican ese acuerdo transaccional y nos dicen exactamente qué es lo que quieren de ese decreto

una administración pública gigante dejando de lado a las empresas y a los trabajadores particulares pues

de mercado como el nuestro sino de regímenes totalitarios aparte de que es absoluta y totalmente insostenible por ese motivo no pueden contar con nuestro apoyo ni para

de transacción muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

generosa y entre el original y

ha querido aquí defender y creo que es el tema de las políticas de contratación de las administraciones públicas con la cual usted no está de acuerdo sea subcontratación contratación recontratación le da igual aquí todo el mundo gestión directa y con unas condiciones de funcionario me ha parecido entenderle eso y creo que

sino entre las propias empresas ya me gustaría saber a mí cómo tiene que funcionar entonces la economía si entre las empresas tampoco se pueden prestar servicios complementarios

mermadora de calidad de los servicios es algo que no comparten por sus hechos y por sus palabras algunos compañeros de su formación en otras administraciones en las que son

de la posibilidad de mejorar en su eficacia y eficiencia y lo que están haciendo no es rechazando esta posibilidad ni publificando todos los servicios que prestan sino incorporando condicionantes al mismo no le va a ser ajena ni novedoso al señor bollain puesto que me pudo escuchar un par de plenos cuál era nuestra posición con respecto

que recuerda cómo reconocíamos que para los socialistas los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de obtención de servicios

sino que creemos que a través de la contratación pública se puede y se debe intervenir en la vida económica y social que se debe de garantizar al mismo tiempo tanto un uso eficiente de los fondos públicos como la consecución de otro tipo de fines de carácter general de interés general o social como puede ser el respeto

no se lo voy a repetir en este pleno porque me parecería excesivo lo que significa el respeto al marco de la negociación colectiva que tiene que desarrollar no los parlamentarios sino los sindicatos

de introducir y que la política de contratación de las administraciones públicas vayan más allá de un criterio economicista a ese objetivo es a lo que responde el respaldo que los socialistas dimos en esta cámara a la ley tres barra dos mil dieciséis de siete de abril en la que se

para recoger medidas que deben contribuir a hacer que la contratación pública sea un respeto

son palabras de su compañero en el ayuntamiento de madrid cuando defiende la utilización de la contratación de empresas privadas incluyendo en ellas este tipo de cláusulas lo considera que es un espacio de respeto de los derechos fundamentales y he de decirle que yo coincido con él

de respeto de derechos que creo que la administración y se lo dije también y se lo voy a repetir hoy tiene que vigilar exhaustivamente porque criterios y esas condiciones se cumplan que tiene que controlar que las empresas a las que adjudica contratos públicos cumplan con las cláusulas que se han introducido y que se han recogido en el contrato

con los incumplimientos que pueda detectar pero eso no significa demonizar la contratación en la administración por tanto no puedo compartir con usted la propuesta original que inicialmente traía a este parlamento ahora esto es el origen de su iniciativa

porque por la poca historia que llevamos aquí lo que sí vemos es que transaccionan y tienen mucha facilidad en transaccionar con eh bildu y poca con el resto de grupos bueno ahí que nos dicen que la administración vele porque las externalizaciones cumplan la normativa vigente porque eso es lo que dice el artículo sesenta

javier el portavoz del partido popular de ese decreto que nos mencionan que se cumpla me imagino ese es el acuerdo regulados de las condiciones de los trabajadores que por cierto firmamos el partido socialista cuando gobernábamos con los sindicatos un solo artículo el sesenta

no para prohibirlas sino para regularlas y también dice y hay un acuerdo posterior del consejo de gobierno también en la época socialista de que tiene que haber un informe trimestral en la que se vaya dando conocimiento de todos esos datos con respecto a los contratos que realiza la administración por cierto esos informes los puede tener usted si quiere porque fueron traídos a este parlamento a petición del grupo socialista

legislatura y los podrá localizar perfectamente si los busca luego nos pide que se haga un estudio que por cierto

aquí nos han venido a decir que cuesta lo mismo o que no hay un mayor coste por publificar determinadas gestiones y por lo tanto si lo saben a ciencia cierta el estudio lo tienen entonces me imagino

y la verdad lo que quieren luego es que hagamos un plan para que los servicios y eso lo ha dicho usted aquí muy claro y yo le agradezco la claridad se presten de forma directa bueno

el mix al que hemos llegado y sabiendo usted que yo no comparto que todos los servicios se tengan que prestar de forma directa ni creemos que la contratación o la gestión indirecta sea el demonio pudiera intentar en estos cuatro minutos que me quedan argumentar nuevos ejemplos para intentar decirles que la gestión indirecta pues no es menos eficiente que la gestión directa ni menos garantista que hay servicios que serían de difícil encaje con recursos propios o imposible pero he pensado que mejor no lo hago y que lo que voy a hacer es devolverles a ustedes la pelota vale y lo hacemos al revés le dejo a los dos grupos proponentes a podemos y a eh bildu que intenten convencerme con hechos

si en alguna de las instituciones en las que gobiernan o han gobernado sean grandes o pequeñitas me da igual que haya sido una diputación un ayuntamiento o una comunidad autónoma

y gestionan de forma directa todos los servicios y no recurren a la contratación si eso me lo pueden decir entonces me convencerán en que lo que están diciendo aquí es algo

como cuestión previa quería hacer un pequeño matiz al igual que han hecho

en realidad consideramos que la iniciativa original la

falta de rigor en cuanto a conceptos jurídicos entendemos que mezcla

contratación pública en sí con la externalización es decir con la gestión directa y ambos tienen regímenes jurídicos diferentes por lo tanto

por lo cual entendemos que hay una confusión de conceptos

que la iniciativa ha sido evolutiva que iniciaba hablando de la subcontratación y sin embargo ha terminado hablando de un convenio un decreto el decreto ochenta y tres barra dos mil diez que en realidad es el regulador de las condiciones de los funcionarios de la administración general

la evolución de la propuesta es legítima y nos centraremos en el fondo así

sobre el acuerdo de la mesa general pues bien este decreto se cumple y se respeta sí se cumple y se respeta

el acuerdo firmado establece sobre las externalizaciones como hemos dicho el acuerdo

pero en ese artículo concreto en el artículo sesenta habla de las externalizaciones y dice la administración atenderá preferentemente con medios propios los servicios que precise para el desarrollo de su actividad es decir preferentemente con medios propios esto así se hace preferentemente con medios propios ese artículo limita las externalizaciones

pero en ningún caso las prohíbe y así actúa el gobierno vasco las externalizaciones cuando las hay si es que las hay

lo que en su caso se externaliza son servicios que no corresponden con la función propia de la administración que se trate y son de tipo auxiliar y complementario con esto no queremos decir

no tiene importancia esos servicios serán necesarios para la administración que se trate pero

la función propia de la administración que se trate tanto

en la escuela o en la administración general misma

hay que decir que obviamente apostamos por una administración cien por ciento pública independientemente de que en algunos supuestos concretos pues haya externalizaciones con posterioridad al dos mil diez hay otros acuerdos como ya se han nombrado

un acuerdo por el que se aprueban las instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de servicios este

gracias a la publicación de todos los contratos en el registro vasco de contratos públicos el conocido revascon

a la información sobre la contratación de todo el sector público vasco en tiempo real la información está permanentemente actualizada además tenemos también el perfil del contratante

hay que destacar así que el gobierno vasco es pionero en materia de contratación siendo un referente

además el gobierno vasco emite informes sobre los contratos celebrados antes con carácter trimestral y ahora con carácter anual en este sentido cuando se pide que se realice en la proposición en la última proposición en la que

se realice un estudio para aflorar la totalidad de los servicios que han sido externalizados y sus costes y sigue tenemos que decir que no hay que aflorar nada aflorar la totalidad de los servicios no hay que aflorar nada todo es transparente

con los instrumentos que ya existen con lo cual no entendemos necesario la realización de este estudio

nuestro gobierno tendrá cosas que mejorar siempre hay cosas que mejorar pero lo que no se le puede achacar en oscurantismo

por otro lado sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras nosotros al igual que ustedes queremos que se cumplan y que sean dignas para todas las personas ya sean medios propios o sean personal de las empresas contratadas

en este sentido en las externalizaciones los pliegos que rigen cada contrato establecen obligaciones del contratista en materia laboral de seguridad social y de seguridad y de salud en el trabajo estando la empresa contratista obligada al cumplimiento de dichas disposiciones legales reglamentarias convencionales vigentes en dicha materia el incumplimiento supondrá directamente causa de resolución del contrato

en este sentido el gobierno vasco hace ya unos cuantos años que determinó que dentro de

la legislación básica del estado determinó una serie de parámetros o cláusulas

para que las contrataciones o las externalizaciones en el caso que se realicen se realicen con la máxima garantía

era una iniciativa parlamentaria se aprobó la resolución

sobre incorporación de criterios sociales y ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y su sector público

en este mismo sentido partiendo de una iniciativa legislativa popular y tras un largo proceso de diálogo y negociaciones entre los grupos parlamentarios

para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública

las personas que las prestan son el capital principal mejorar sus condiciones de trabajo y contar con suficientes dotaciones es totalmente necesario y así lo consideramos

es buena y si hubiera en algún momento alguna irregularidad se corrige

condiciones laborales dignas para todas las personas así

cuando las hay están sometidas a controles son limitadas no suponen la destrucción de empleo para nada

cien por ciento públicas y de calidad eta horregatik guztiagatik ez dugu ekimen hauek babestuko

tranquilamente que ustedes estén a favor de no aprobar esta enmienda a la que hemos llegado entre euskal herria bildu y nosotros al fin y al cabo cuando uno presenta una proposición no de ley pues tiene que ser flexible

a las distintas sensibilidades y entiendo que no lo aprueben ni ustedes ni el partido socialista ni el partido popular ya que la externalización evita conflictos laborables

lo decían en el dos mil catorce el partido socialista y el partido popular en el dos mil catorce decían el partido socialista y el partido popular que

a empresas afines al pnv y bueno por eso qué pasa del dos mil catorce al dos mil diecisiete cito textualmente el partido socialista decía no parece que el gobierno esté cumpliendo su compromiso de optimizar los recursos de la administración el compromiso de no externalizar necesidades habituales

porque seguimos por la misma senda por poner un solo ejemplo podríamos nombrar las masivas externalizaciones

externalizaciones en marcha por valor de once millónes de euros externalizaciones en marcha en necesidades habituales y permanentes como decían ustedes

en la cocina en el restaurante en la lencería en la lavandería en la limpieza en la seguridad

necesidades habituales y permanentes dice usted señora larrauri

todos todos los sindicatos dicen lo contrario alguien está mintiendo las

once millónes de euros para externalizar todo eso que está en marcha en el hospital por poner un solo ejemplo de urduliz el partido popular decían ustedes en dos mil catorce

y que hay una sospecha sobre las externalizaciones ya que anteriormente se ha comprobado

para favorecer a determinadas empresas o amiguetes cito textualmente qué problema hay en realizar un estudio por eso nosotros entendemos que es necesario aparte de cumplir el decreto lógicamente porque es triste pedir en un parlamento que se cumpla la ley que los sindicatos dicen inciden

que nos ofrezca la realidad de las externalizaciones en nuestro país o como decía el propio sémper pequeñas corruptelas que son legales textualmente y así con un estudio

sobre sendos pilares para poder por un lado optimizar los recursos de las administraciones públicas y por otro lado

óptima para dotar unos mejores servicios públicos a la ciudadanía dice usted señora larrauri que apuestan por una administración

tener las comparaciones y elegir cuál es la vía óptima para dotar de unos recursos óptimos unos servicios públicos

o cien por ciento público es tener un estudio un informe si es transparente qué miedo hay en traer un informe a esta cámara traigamos un informe

un estudio que se compare cómo sería si fuera publificado y cómo si fuera privatizado y elijamos no estamos para eso para comparar cuál es la mejor

y lógicamente que se cumpla el decreto un decreto que sistemáticamente se está incumpliendo y no lo digo yo lo dicen los sindicatos eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señor bollain nosotros no hemos cambiado de opinión desde el momento en que se ha referido usted a las citas de

el hecho de que se hayan producido contrataciones

a los que adjudicaban eso no quiere decir que haya que eliminar todas las contrataciones

nosotros hemos dicho que había cierto tufillo se ha dicho históricamente pero no lo décimos nosotros salga usted a la calle y en determinados ámbitos pregunte las sonrisas van a ser francamente manifiestas

pero eso no quiere decir que tengamos que eliminar todas las subcontrataciones y todas las privatizaciones de los servicios

los titulares en ese momento de las administraciones públicas

lo que hay hacer es vigilar que las cosas se hagan bien la legislación es bastante estricta y como es bastante estricta lo único que tenemos que hacer es controlar

pero centrándonos en los diversos temas que nos ha traído usted hoy aquí a parte de la subcontratación le voy a dar

de por qué no vamos a aprobar el acuerdo al que han llegado en primer lugar porque yo entiendo que lo que tendría que haber hecho usted es retirarla porque si presenta

y resulta que se la enmiendan hablando de pájaros y flores de otras cosas completamente distintas y usted se olvida de la suya lo lógico y lo normal es que

y que presente bildu la suya sobre la externalización y entonces debatiremos sobre la externalización eso es lo que entiendo yo que tendría que haber hecho usted como usted no lo ha hecho nosotros vamos a votar en contra

los tres puntos a los que ustedes han llegado de acuerdo son contradictorios entre sí por un lado está pidiendo que se respete

y obligar al gobierno a que lo cumpla no dicen en qué esa indefinición es un poquito peligrosa en todo en todos esos artículos bien perfecto eso es objeto de otro procedimiento iba a decir procedimiento la cabeza a otras cosas de otro asunto de otra intervención en este pleno pero en ese punto sesenta que se cumpla lo que dice ese decreto

cómo deben mantenerse qué hay que vigilar y qué hay que promover para que esas externalizaciones continúen

porque es que la ley no impide que se externalicen o privaticen

no se cumpla no hay que cumplirlas si no nos gusta las modificamos pero en este caso hay que cumplirla pero es que usted se va al segundo punto

acuerdo acuerdo acuerdo por llamarlo de alguna manera de ese texto en el que han fagocitado sus intereses iniciales

dice que lo que hay que estudiar estudios que ya están hechos

esas externalizaciones el decreto nos dice que pueden existir y en qué condiciones y ustedes dicen que no que se reviertan y que se preste el servicio por parte de la administración mire eso es una barbaridad jurídica y real

en un aspecto concreto al que usted además se ha referido un hospital

a todo el tema de los hospitales y de las residencias de la noche a la mañana vamos

vamos a publicarlas todas mire no hay economía suficiente si ya atinamos mal

para ver la recaudación y mantener el sistema que tenemos si no nos llega el dinero porque no reducimos el gasto corriente y porque el capítulo primero crece en contra de lo que hacen todas las administraciones de españa en lugar de disminuir cómo vamos a mantener este estado y cómo van a ser la calidad de los servicios que debe el gobierno prestar a los ciudadanos es absolutamente imposible los estudios que usted pide están hechos o deberían estar hechos en cumplimiento de la ley

y anualmente y ahí tienen que estar es una obligación de transparencia luego no pidamos gastar dinero o tiempo de los funcionarios en hacer otros estudios que ya están encima de la mesa y aparte de que ya están hechos cumplamos ese decreto no revirtiendo esas externalizaciones porque el decreto las permite por eso
porque es contradictorio y porque pide cosas que ya están hechas vamos a votar en contra muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

cuando no hay argumento se entra en la descalificación yo no me como nada bueno sí todos los días desayuno como y ceno y el partido socialista tampoco nosotros acordamos igual que hacen ustedes

entonces no me suele gustar entrar en debates de este asunto sobre todo cuando lo que vengo aquí

cuando llegó eh bildu sabe que se pactó el partido socialista con los sindicatos en el año dos mil diez hablamos de una utilización preferente de no externalizar servicios que fueran

y establecimos unos criterios y los publicamos es que no hemos cambiado esto es del dos mil diez

entonces a mí que me hablen de incoherencia me pone nerviosa fundamentalmente cuando no hay otro argumento más que tirar

aquí se estableció la preferencia no la exclusividad el problema lo tiene usted cuando pacta

pública directa con funcionariado que es lo que él tiene como objetivo lo que podemos tiene como objetivo

que parece ser que no es lo que usted dice porque aquí ha venido a decirme que bueno podría ser es más hay frases cuando se externalizan los servicios no tiene porqué ser bueno o malo es lógico que las empresas quieran ganar

claro y lo tiene que decir usted aquí porque cuando han gobernado ustedes lo han hecho

lo que hicieron fue esas residencias que tenían los ayuntamientos y que no les correspondía tenerlas las asumió la diputación foral que era lo que tenía que haber hecho con el funcionariado que tenían o con los servicios externos que tenían es decir con un techo de gasto lo que pasa que claro

y cuela entonces tengamos un poquito de seriedad y no entremos a la descalificación porque a mí no me gusta en el debate parlamentario entrar en descalificación y desde luego tampoco la suelo permitir por otro lado se habla del tema de la calidad y del cumplimiento hay informes e inspecciones es decir no solamente hay informes hay inspecciones y lo que tendrán es que funcionar y ponerse en marcha mecanismos correctores porque no siempre todo se hace bien eso es lógico

nadie puede hacer todo bien y nadie dice

ni en ningún otro sitio lo mismo que imagino que dirán ustedes dirán los señores de bildu dirá en partido popular y dirá el partido nacionalista vasco lo que décimos es que se respete la normativa

y no creo que tampoco sea podemos un partido que quiera llevar las cosas al absurdo

pero bueno yo eso lo entiendo ya me dijo usted porqué estábamos hablando otra vez aquí de esto y perfecto

y de todos los servicios médicos relacionados son públicos de gestión directa y no son están con contratas aquellos que son

y que se mantiene es decir aquellos servicios complementarios podrán

de los que constituyan funciones propias de la misma es decir no vamos a contratar servicios médicos verdad pero podremos algunos otros como

porque eso es lo que hacen ustedes allá donde gobiernan me gusta y está muy bien venir a la tribuna yo también podría aquí tener mayores lindezas o ahí donde no gobernamos decir mayores lindezas pero a veces hay que tener coherencia coherencia en oposición y coherencia en gobierno

en la legislatura que nos queda en este debate defiendan lo que allí donde gobiernan

cómo diría yo de punto intermedio porque es verdad no todo es negro ni todo es blanco hay grises pero lo que ustedes nos han propuesto hoy aquí en su transaccional

al señor bollain cuando ayer le decíamos oye este punto tercero tendríamos que modificarlo porque no podemos

eskerrik asko berriro ere mahaiburu andrea bueno señor bollain tras escucharle me quedo perpleja no tienen claro si quieren una administración cien por ciento pública

nosotros queremos una administración cien por ciento pública me llama la atención señora ubera

parlamento que incluía cláusulas o aspectos de las condiciones laborales bueno como sabe este

a través de la contratación pública modificar la legislación

del dos mil doce y bueno yo insistir

por una administración pública están diciendo que las externalazaciones producen privatización de la administración la merma en la calidad de los servicios y la destrucción del empleo pues bien eso no es cierto en ninguno de los aspectos la externalazaciones si las hay son puntuales como se ha dicho

a servicios de tipo accesorio complementario urduliz no es menos público porque tenga la lavandería

contratada y la lavandería y la limpieza son importantísimas pero el hospital de urduliz es cien por ciento público

corresponde a un modelo de gestión que está demostrado que funciona y no hay nuevas externalizaciones

otro matiz que siempre quieren llevar la externalizacion merma la calidad pues no la calidad de los servicios no se altera y es buena

en otro sentido la externalización privatización hay una tendencia a la privatización de favorecer hay un plan organizado para favorecer la privatización para favorecer al sector privado pues no es cierto

eso es una manipulación es intentar confundir a la población

pero que una externalización puntual supone una privatización pues no es cierto

sigue siendo pública la escuela es pública y el ayuntamiento es público si tiene un servicio de limpieza externalizado en cuando que la externalización produce destrucción de empleo obviamente no es cierto nunca

algún servicio nunca ha habido una amortización de ninguna plaza y además en este sentido estamos viendo últimamente y lo hemos oído en las comparecencias de los consejeros

distintas ope para desarrollarse a lo largo de esta legislatura

las administraciones públicas vascas en general de distintas administraciones

hay otra ope prevista para dos mil dieciocho osakidetza que es la mayor empresa de este país
es el principal empleador con una plantilla estructural de veintiséis mil personas isiltasuna mesedez ochenta y cinco por ciento son mujeres y
en ningún caso se ha producido amortización de plazas en ninguna de las categorías profesionales y además el sesenta y nueve

se han convocado cuatro ope con un total de siete mil ciento setenta y cinco plazas de todas las categorías y pese a la

se garantiza o se pretende una estabilidad y una calidad en el empleo hay una ope de dos mil quince con dos mil catorce plazas en marcha

y la idea es seguir según dijo el consejero seguir haciendo ope cada dos años que es cuando se van resolviendo además para cumplir el objetivo de estabilidad el departamento de salud apuesta por cubrir la contratación temporal con nombramientos interinos

en cualquier caso está claro que hay una tendencia a la creación de empleo público o así

la administración pública vasca sigue siendo pública y

no vamos a apoyar esta iniciativa ni la enmienda acordada eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea eztabaida amaitu da

gracias señora presidenta egun on guztioi mucho hemos debatido

en la pasada legislatura y lamentablemente hemos debatido no para cosas positivas de e i te be hemos debatido de los múltiples problemas que se han detectado en el ente debatimos de la deficiente gestión en la dirección del mismo

competentes que constituyen el personal de e i te be debatimos también en esta cámara en numerosas ocasiones del ere encubierto que se hizo en la radio y que provocó

debatimos de la caída de audiencias de e i te be las audiencias que es la única y principal guía de cualquier medio de comunicación privado pues en este caso

si el servicio que están ofreciendo se considera de interés público pero es que aquí no se pasa ni a un segundo

han ido cayendo mes a mes hasta alcanzar cuotas cuya media no pasaban del diez por ciento en cuatro años hemos perdido un veinticuatro por ciento de audiencia en este momento no somos

ni siquiera para los euskaldunes el ente acaba de cerrar dos mil dieciséis con las peores cifras de su historia con unas cuotas de pantalla mínima que apenas superan como digo el siete por ciento no llegan al cien del share de su cadena principal e te be dos

en este momento e i te be tampoco creemos que cumpla con los objetivos de normalización lingüística de promoción del euskera

rondan el dos por ciento porque los vascos no se sienten identificados con su contenido en una época en la que la mayoría

debatimos de los problemas del ente para responder a principios de objetividad imparcialidad

y de los valores democráticos hablamos también en la pasada legislatura del sesgo político ideológico siempre del mismo lado del lado nacionalista que tienen no solo ya los informativos auténticos publirreportajes del gobierno

del ente ya sean programas de tertulia documentales etcétera siempre se tratan los temas que interesan no

sino aquellos que son prioritarios para el nacionalismo y no solo el sectarismo está en los temas sino también en la forma de tratar esos temas cuando se habla del resto de españa parece hablarse de un país extranjero eso sí euskadi la forman también navarra y el sur de francia cuando se habla de diputados o senadores vascos siempre

hemos hablado también de los problemas económicos de la cadena solventando siempre con más fondos públicos

nos encontramos con una falta de planificación estratégica con una ausencia de producción propia de calidad el capital humano que aporta e i te be es de una calidad

tienen una calidad enorme pero la plantilla está absolutamente poco optimizada y ello ha llevado al recurso ingente a productoras siempre las mismas vinculadas a los mismos una elección que en muchos casos no siguen principios de productividad medida en términos de audiencia sino criterios bastante menos transparentes

de programas de éxito de cadenas nacionales que salvo en honrosas excepciones

pero un fracaso que nos cuesta mucho a todos los vascos todo esto tal y como décimos en la justificación ha traído consigo la dificultad de adaptarse a los nuevos retos con la llegada de nuevos canales

integrales revisaban su modelo su estructura su dimensión trataban de adaptarse a los nuevos retos tecnológicos aquí hemos ido a rebufo y los cambios que se han hecho han sido parciales no olvidemos que la ley del ente tiene la edad que tiene por ello creemos que se debe abrir un debate en profundidad sobre los principios

refuerzo de su carácter de servicio público sobre su organización sobre su funcionamiento sobre su modernización

su incremento de transparencia sobre mayores controles públicos sobre participación por eso como decía creemos que es necesario un replanteamiento del ente e i te be que también lo hablamos en la anterior legislatura que se intentó pero que no fue posible hacerlo

nosotros en nuestra iniciativa original planteábamos una comisión especial para la reforma de e i te be para reformular el modelo de gestión de funcionamiento y control público

teniendo como referencia otros modelos del panorama audiovisual

transaccional con el partido nacionalista vasco y el partido socialista a quien agradezco desde ahora la disposición que desde el primer momento han tenido para llegar

y en el primer punto de esa enmienda recogemos el testigo como hemos dicho antes de lo que hicimos en la legislatura anterior concretamente en julio de dos mil dieciséis se acordó abrir un debate con el objeto de abordar la reforma integral de e i te be para conseguir una mayor eficiencia en la prestación del servicio público y de la televisión vasca por lo tanto ese debate es el que tenemos

también proponemos reformar el ente para reformular el modelo y adaptarlo a los nuevos retos en el marco de una ponencia

la sostenibilidad y eficiencia del ente instrumentos de elección control

adaptación de su oferta a la nueva realidad sociolingüística así como a nuevos cambios

los cambios en el modelo empresarial organizativo fomento y apoyo a la industria audiovisual vasca y por último

defendemos una metodología participativa teniendo en cuenta no solamente informes que se puedan realizar o se han realizado por upv sino también todos los documentos y estudios previos

se llevará a cabo el trabajo creemos por tanto que debe de ser una ponencia abierta una ponencia en la que participe cuanta más gente mejor que participen expertos profesionales del medio en las que se pongan sobre la mesa otros modelos de referencia

como he dicho tengamos en cuenta estudios ya realizados y si fuera necesario encargar estudios nuevos en el que se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores y profesionales del medio

de transacción y correlación alguna de las cuestiones que planteaba como el consejo audiovisual el consejo social o bien la modificación de la propia ley del ente será algo que habrá que debatir en la ponencia y que de los trabajos que en la misma se realicen como conclusiones

que probablemente será imprescindible la modificación de la ley del ente esta ponencia

adaptada a las nuevas demandas de los ciudadanos transparente controlada públicamente sostenible que apueste por la calidad por las capacidades de sus profesionales y dirigida mirando a su carácter como servicio público mirando

debe ser llegar a un acuerdo entre todos los políticos para que e i te be deje de ser un instrumento al servicio de los políticos para convertirse en un instrumento público dos cuestiones importantes a juicio de nuestro grupo deben deducirse de esa ponencia en primer lugar es necesario despolitizar e i te be es necesario que se entienda que unos medios de comunicación no pueden estar al servicio de un partido o de un gobierno

debieran de ser unos medios de comunicación independientes al servicio de

no de como digo al servicio del nacionalismo o del gobierno de turno sino al servicio de toda la sociedad vasca y no solo de una parte de ella en segundo lugar

un modelo de medios que consiga ser referente entre todos los vascos tanto para la información como en el entretenimiento

en nuestra oferta local deportiva cultural y social y un medio que potencie una de nuestras lenguas el euskera e i te be es un ente autonómico y eso es lo que debe primar e i te be debe ser más competencia de medios locales que de medios nacionales

de los vascos con el mayor ente público de comunicación de euskadi como decía sobre todo con e i te be uno cuando siete de cada diez jóvenes

y les voy a poner algún ejemplo de por qué a nuestro juicio no se centran en los contenidos locales en las tertulias políticas los temas a tratar en muchísimas ocasiones

lo que suceda en el parlamento casos de corrupción que evidentemente se tienen que tratar pero siempre nunca los de euskadi siempre los de fuera y desde luego si hay algo que es incómodo para este gobierno eso no se trata y hay que señalar que para ver comentarios de política nacional

los desayunos de la primera el programa de ana rosa que entran en competencia con nosotros desde luego en esos programas no se tratan los temas específicos de aquí esto es lo que debiera de hacerse otro ejemplo en e te be uno aporta más audiencia el eguraldia que cuatro horas de programación todas juntas

lo que le interesa es la información de aquí de lo que pasa en euskadi el hecho por ejemplo de tener en cada territorio histórico equipos de fútbol y baloncesto en las máximas categorías nacionales no explica que no se ofrezcan

antes o que se dedique tampoco tiempo en los servicios informativos a cada equipo y esa

lo que sostiene muchas ocasiones la audiencia de etb uno es el partido de pelota aquí

a lo que no es en esta ponencia queremos contar como les decía con los mejores especialistas en los diferentes sectores pero estoy segura que muchos convendrán que centrarse

centrarse en la promoción del euskera porque es la única cadena que puede hacerlo debe de ser

porque son los vascos quienes financian con sus impuestos y quienes sin embargo tal y como califican las audiencias no ven a e i te be como un medio de referencia en euskadi

ese plus de emitir en euskera ese plus de hablar de los temas de aquí de los temas locales de los temas de los vascos

de lo que sucede en cada territorio histórico de lo que sucede en cada ciudad de lo que sucede

de lo que sucede en definitiva en el entorno más cercano de cada uno

los vascos se merecen una e i te be que se ocupe de sus asuntos de los que le interesan no de los que interesan a la dirección del ente

donde podamos hablar de todo esto donde podamos discutir con expertos cuál es el modelo periodístico que queremos para e i te be

sólidos y reales que e i te be no puede ser un medio propagandístico del gobierno de turno

un medio de comunicación y entretenimiento para todos los ciudadanos para los que votan al pnv y para las que votan al resto del partido del espectro vasco porque como hemos dicho muchas veces

para que e i te be como decía sea una cadena solvente sostenible transparente comprometida

entretenida y de calidad nosotros queremos trabajar para que eso sea así porque creemos que se lo debemos a los ciudadanos y porque creemos que realmente otra e i te be

radiotelevisión pública vasca y de la necesidad de encarar un proceso de reforma integral de la misma al parecer en esta idea estamos todas de acuerdo lo cual no es poco lo que son pocas tengo la impresión son las ganas de algunos grupos de que esa reforma llegue

materializarse en elkarrekin podemos ya defendimos durante la campaña

de comunicación que cumplan fielmente su misión de servicio público garantía de profundización democrática y de formación de la ciudadanía informada y crítica y se lo anticipamos con este tema vamos a dar mucha guerra en todo caso nos alegra como decía que vayamos a tener ese debate aun a sabiendas que no vamos a estar de acuerdo en cuáles son las claves del mismo

de la misma forma que si hablamos de transparencia rendición de cuentas o participación las declaraciones de intenciones están muy bien pero poco aportan si no se dan los pasos para ir de las palabras a los hechos

y sobre las que invitamos hoy al resto de los grupos a debatir sin demora proponemos las siguientes medidas despolitizar el consejo de administración

que replica el equilibrio de fuerzas del parlamento y que otorga a los partidos la potestad

no hay más que ver el acuerdo alcanzado esta semana para su renovación que no compartimos en absoluto nosotras

a seis del número de personas propuestas elegidas por el parlamento siempre respetando la paridad de género las personas candidatas a formar parte del consejo de administración deberán acreditar

también proponemos la creación del consejo social como órgano de dirección y de control de e i te be compuesto de forma paritaria por supuesto

este consejo elegiría a tres personas para el consejo de administración también creemos importante la participación de las personas que trabajan en el ente público

y que deben de estar representadas en el consejo

mediante convocatoria pública al director o directora del ente en base a su currículum y al proyecto que presente bajo los principios de igualdad mérito y capacidad

y una vez hecha la designación esta deberá ser ratificada por dos tercios del parlamento por supuesto el nombramiento debe realizarse con criterios de profesionalidad tras un proceso selectivo público

y transparente al personal directivo de e i te be vayamos

un paso más allá de las buenas intenciones y empecemos a poner sobre la mesa propuestas concretas y empecemos seriamente a acotar el plazo para su debate y aprobación fíjense la legislatura pasada fue una ocasión perdida

y que nada cambie y eso a pesar de que la reforma de e i te be es urgente y vamos tarde

no olvidamos no podemos hacerlo no nos lo perdonaríamos hoy toca recordar que e i te be ha padecido el único ere de todo el sector público vasco

cuya judicialización supone unos costes para las arcas públicas

como ustedes bien saben contamos con una metodología participativa que la universidad del país vasco diseñó a finales de la legislatura pasada a solicitud de esta cámara

comisión que no cumplió con su mandato como ya hemos dicho no hace falta más que leer lo aprobado el parlamento vasco creará antes de la finalización del actual periodo de sesiones una comisión especial que siguiendo la metodología del proceso participativo diseñado por la upv siente las bases de la reforma de e i te be

a fin de emprender las iniciativas de reforma deberían ustedes explicar hoy aquí porqué no cumplieron con lo acordado en esta cámara

es pertinente exigir responsabilidades hoy como el día de la marmota algunos partidos vuelven a repetir una y otra vez la defensa de una reforma de e i te be

estamos hablando de una reforma que defienden solo de cara a la galería pensamos que es imprescindible aprovechar el excelente trabajo realizado por la upv y poner en marcha

no solo por conocer la opinión y las propuestas de la ciudadanía sino también de las personas profesionales del sector las personas trabajadoras de e i te be y los análisis y propuestas de las personas expertas en medio de comunicación públicos seguramente ese trabajo ahorraría mucho tiempo y recursos a la ponencia cuya creación debatimos hoy aquí

para contar con esta metodología hoy quieren guardarla en el cajón y volver a hacer

y postergar unos años más la reforma de un medio de comunicación

porque de lo que se trata es de saber si la voluntad de iniciar un debate o reflexión sobre la reforma integral de e i te be es una voluntad sincera de facilitar las medidas legislativas imprescindibles

siendo producto de debate de la reflexión no se quede solo en eso en este sentido pedimos un compromiso al resto de grupos sencillo de asumir fijar un plazo de año y medio como duración máxima de la ponencia y hacer que sus trabajos

que no es más que cumplir con lo acordado en la legislatura pasada y si no expliquen por favor a la ciudadanía porqué hay que incumplir lo dicho en la anterior legislatura por otra parte también invitamos al resto de partidos a que asuman un compromiso sobre la reforma de la ley de e i te be de forma

como les decía antes nosotras ya hemos empezado a trabajar en este sentido

de la mayoría de esta cámara cuando traigamos el debate de la propuesta de la ley mencionada por otra parte pensamos que defender un nuevo modelo de

en la eficiencia la independencia y la transparencia significa acordar la creación de un órgano independiente de control externo

para lo cual es imprescindible contar con una ley vasca de comunicación demandada desde hace mucho tiempo por el sector

observamos que el gobierno no tiene voluntad real de concretar un plazo ni de servirse del diseño metodológico de la universidad del país vasco algo que resulta sin duda sorprendente si tenemos en cuenta que fue un encargo repito de este parlamento no podemos seguir repitiendo una y otra vez que estamos a favor de un debate que sientan las bases de la reforma de e i te be

la participación y la gestión eficaz y luego

concretas en un periodo de tiempo razonable estamos en disposición de conseguirlo antes de que acabe esta legislatura pero al parecer la voluntad de hacerlo de forma eficiente y eficaz es nula por parte de algunas por tanto ratificamos la necesidad de abordar con urgencia la reforma de e i te be y defendemos la creación de una comisión especial que debata la reforma del ente que cumpla con lo establecido en el diseño de una metodología participativa para la reforma de e i te be elaborado por la upv

y eficiencia del ente la despolitización del ente implementando instrumentos de elección control y transparencia de sus órganos de dirección la adaptación de su oferta a la nueva realidad sociolingüística así como los cambios de y nuevos usos tecnológicos

el papel de e i te be en la normalización del euskera la producción y el tratamiento de la información

de la ciudadanía en la gestión de e i te be eskerrik asko eskerrik asko arana

badirudi inork ez duela bazter batean geratu nahi porque esta vez parece que sí porque antes no era así esta vez sí hay voluntad común de hacer posible un debate de fondo para conseguir

y a las nuevas demandas de la ciudadanía que recupere su carácter público

porque algunos sí hemos hecho cosas antes de llegar aquí algunos sí hemos hecho cosas

modestamente hicimos pública una reflexión que nos llevó a una conclusión hoy compartida era necesaria

imprescindible de la radio y televisión pública vasca porque en aquel momento las socialistas nos paramos a pensar cuál era el camino recorrido y cuál era el diagnóstico

y que teníamos que pasar y dejar más allá de los debates personalistas

una u otra determinada gestión esa es la reflexión que hicimos entonces y que mantenemos ahora

nosotras sí compartimos por tanto ahora con muchísimas más personas y más grupos en esta

sea donde se dé el debate de reforma de la radio y televisión pública vasca cierto es que en aquella reflexión que realizamos hace dos años no solo decíamos

también hablábamos de propuesta de cambio concreta para los y las socialistas que eran imprescindibles o necesarias

las modificaciones relacionadas con la estructura empresarial organizativa los procedimientos de transparencia para sus órganos de gobierno y sociedad

las competencias y características de sus órganos de dirección la profesionalización de la dirección y la creación de órganos asesores y nos pronunciamos sobre ellas en aquel momento porque sabemos que una reforma integral como usted bien ha dicho también desde elkarrekin podemos pasa por tocar determinados ámbitos en la radio y televisión pública vasca

un debate para repensar de arriba abajo la radio y la televisión pública vasca implicará modificaciones

lo sabemos las que se han realizado hasta ahora como las que se han hecho muy puntuales han sido limitadas y casi sin éxito fueron importantes en su momento pero ahora son insuficientes las que se han intentado después que también han sido parciales

carácter de darle la vuelta de arriba abajo a la radio y televisión pública con esos objetivos que se han dicho y que muchos de ellos compartimos por tanto de verdad

queremos una reforma integral de la radio y televisión pública vasca

que señalaba antes de mencionar que no mencionaba el estudio de la upv que pactamos nosotros las socialistas vascas con el grupo eh bildu

para poder ser tenido en cuenta además de eso podemos compartir incluso muchas de las apuestas que usted hace porque en nuestra opinión una vez que se haga

alguna de sus propuestas como las que nosotros hicimos hace dos años

y que muchas de ellas como usted ha dicho van a ser a través de reformas legislativas no tenemos duda de eso lo único que estamos haciendo es decir que el momento este no es un momento menor después de los debates que ha habido con respecto a la radio y televisión pública vasca porque aquí no había tal consenso para que hubiera una reforma integral

esa reforma se hiciera dentro del parlamento y permítame que la política vasca cuando se producen hechos

ese gran consenso para la reforma se producen en este parlamento y se producen con respecto a un servicio público que entiendo

de nuestra opinión personal valoramos y queremos poner en valor

yo entiendo que tenga usted sus precauciones nosotras también la tuvimos en su momento pero creo que es valorable

y de verdad que es valorable no solo por lo que supone sino por todo lo que ha supuesto después de lo que se ha pasado con respecto a este tema

integral en el que podemos hablar no sé si de consensos pero sí de ponernos a hablar y no de trifulcas y de fuegos a mí me parece quizás soy excesivamente optimista algo valorable

nos vamos a volcar no tenga ninguna duda nos vamos a volcar en el trabajo de esa ponencia

los grupos se sienten establezcan el plan de trabajo teniendo en cuenta para la metodología participativa tanto el estudio

y en función del plan de trabajo podamos acordar el calendario que obviamente por la urgencia y la necesidad que tiene el tema y por las personas implicadas porque como dice usted hay personas implicadas lo tendremos en cuenta no nos negamos a dar rapidez a implementar los ritmos necesarios

lo que entendemos es que por encima del plazo concreto

a definir el plan de trabajo y luego fijar un calendario que sí tenga esos ritmos que usted me manifestaba o manifestaba en su discurso además lo hago ya me ha oído desde

la empatía con muchas de las peticiones y de las valoraciones que han realizado

que e i te be sigue siendo algo de todas las vascas y si sigue siendo algo que nos incumbe nos tiene que preocupar y ocupar y que queremos lo que no ha sido hasta ahora pueda serlo en el futuro un referente

y una impulsora de los valores democráticos y de la cohesión social un autentico motor

para crear contenidos de calidad y adaptados a los nuevos formatos tecnológicos y que lo haga contando con todos los profesionales de la casa que son grandes y muchos

los que hacen informativos y los que dejan de hacer los informativos y aporten lo que sepan para la mejora del servicio ese es el compromiso del partido socialista

la enmienda lo que no había antes hay ahora

que no había antes por mucho que yo sea nueva me he preocupado de mirarlo y no es esto de que volvemos a decir lo mismo de verdad no había consenso

por favor no lo había ahora lo hay lo hay para que se haga parlamento con todos los grupos políticos los que estaban y los que han venido lo hay para hacerlo con los ritmos necesarios para atender a nuestra

vasca y a los trabajadores que están en ella y para atender sobre todo a la audiencia

esperando esa mejora del servicio y que nosotras y nosotros hagamos nuestro trabajo gracias

estamos en la defensa de un servicio público un servicio público que es indispensable para toda sociedad moderna

los principios que inspiró su puesta en marcha creo que no es tampoco baladí el retomar y el reformular o el releer mejor dicho la ley

es muy sencilla y tiene un preámbulo precioso y yo creo que todos seríamos capaces de suscribirlo en este momento evidentemente tenemos mucho trabajo que hacer pero creo que

cuando queremos reformular algo volver a los orígenes volver a los inicios y volvernos a cargar de ilusión dice el preámbulo

medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo de fomento y difusión de la cultura vasca teniendo muy presente

todo ello como base y fundamento para el adecuado desenvolvimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas diríamos ahora de esta comunidad

hauek acceso universal cohesión social diversidad no solo cultural diversidad cultural diversidad lingüística diversidad funcional

promoción y proyección exterior de nuestros valores de valores de nuestras singularidades de nuestra forma de ver el mundo y también el apoyo

y el fomento de las industrias culturales propias por tanto creo que estamos hablando de algo que merece el mayor

lasai lasai eta tentuz sosegu batekin eztabaidatzeko tenemos un contrato programa un contrato programa que se firmó

de dos mil dieciséis posterior a los debates y casi casi casi a la vez que el informe fue por fin terminado y presentado el famoso informe de la

que está firmado y que nos da una tranquilidad y una capacidad de debatir

pero quiere decir sosegado de qué queremos hacer entre todos con el ente público para que nos dé un servicio audiovisual público tenemos

que marca una diferencia con lo que hemos tenido en los años anteriores porque como ustedes saben perfectamente el último contrato programa

y desde dos mil once se han firmado solamente programas anuales la existencia de un programa plurianual garantiza el desarrollo del trabajo del ente y de sus profesionales de una manera como todos podemos imaginar más planificada más organizada y con unas coordenadas de previsión de proyectos mucho más seguros pero es que además el contrato programa

los compromisos que asume para su prestación las actividades y objetivos a cumplir por parte del ente y las sociedades los compromisos que el gobierno vasco en relación a financiación ha adquirido también los mecanismos de control de ejecución también la financiación

y también por el mantenimiento y por el principio de racionalización de los recursos por tanto creo que tenemos dos claves fundamentales en este momento para abordar este debate

el acuerdo y el contrato programa creo que son dos claves importantísimas que nos permiten trabajar más allá

que haya podido haber en esta cámara es momento de empezar a trabajar porque desde luego los retos que tenemos ante nosotros son impresionantes

que tenga que reformularse que tenga que afrontar retos que tenga que trabajar duramente en reformularse y en rearmarse

pero en todo el panorama audiovisual público

informes últimamente de cómo está el estado de la cuestión en este momento y desde luego ni somos una rara avis

ni tenemos más problemas que otros tenemos unos problemas parecidos con nuestras especificidades

que son de calado y que yo insisto creo que marcan un punto de inflexión y ante los cambios ante los cambios de este calado ante los cambios

suele haber posturas diferentes algunos son pesimistas otros son optimistas los pesimistas

no tendremos más televisión y los optimistas entre los que me cuento

abundancia flexibilidad accesibilidad personalización de accesos estamos ante un cambio de época estoy convencida de que estamos ante un cambio de época en la forma de difusión y en la forma de consumo de los servicios

públicos tenemos por delante una reforma apasionante yo desde luego creo que hemos hecho un trabajo interesante intentando llegar a un acuerdo con nuestra propuesta de transacción se ha unido el grupo popular creo que hemos estado muy cerca de llegar a un acuerdo y creo que más allá de pequeños matices todos estamos de acuerdo en poner en marcha esta ponencia donde debatiremos de una manera tranquila y sosegada eskerrik asko

eta guk adin horretakook televisión españolako ba un globo dos globos tres globos edo la casa

queremos una e i te be adecuada a los tiempos queremos una e i te be en la que todas y todos nos sintamos identificadas queremos una e i te be euskaldun queremos un gran grupo de comunicación del que nos sintamos orgullosas en eh bildu queremos todo eso porque

queremos a e i te be eskerrik asko agirre

señora presidenta y es verdad ahora buenas tardes a todos voy a coger el testigo de la última frase que ha dicho la señora agirre porque nosotros y nosotras desde el grupo popular claro que queremos a e i te be y lo digo

porque parece que cuando el grupo popular pone encima de la mesa determinadas cuestiones que no funcionan bien en el gobierno es que no quiere

que está poniendo encima de la mesa ha pasado con la ertzaintza y mucho me temo que igual puede

grupo político que tenga la tentación de decir al partido popular no le gusta e i te be pues claro que nos gusta e i te be lo que no nos gusta es esta e i te be esta e i te be es la que no nos gusta y creemos que hay que cambiarla además es verdad señora romero este fue un debate

en la legislatura pasada que precisamente fueron los socialistas los que trajeron aquí esa necesidad de reforma integral del ente que no fue posible evidentemente porque no existía el consenso en ese momento pero que precisamente porque consideramos que es un debate importante que es un debate que es necesario

pero tampoco sin pausa que es un debate que debe hacerse cuanto antes para que dé tiempo a hacerlo nosotros es una de las primeras iniciativas que presentamos

la ponencia es un órgano abierto en el que cada uno de los grupos así lo vamos a proponer cuando se haga la metodología de trabajo podremos proponer una serie de participantes de personas que queremos que vengan aquí a contarnos profesionales el propio medio

al margen otros modelos audiovisuales queremos contar con la mayor participación posible

importante un trabajo intenso pero hay que hacerlo bien bien por dos cuestiones fundamentales una

de un servicio público y que como tal debe ser entendido y segundo porque es un servicio

que los vascos pagan con sus impuestos y que los vascos lo que pagan con sus impuestos tienen que ver devuelto con una televisión de calidad una televisión con la que se sientan ilusionados precisamente como esos primero momentos que usted decía

está agotado yo

a la señora arana tengo que decirle que desde luego por parte de esta parlamentaria ni de nuestro grupo no hay ninguna intención de ganar tiempo en absoluto

queremos que la ponencia empiece cuanto antes que empiecen los trabajos cuanto antes

hay que optimizar a los trabajadores del ente hay que darles voz a los profesionales a los muchos y buenos profesionales que hay en este momento en el ente hay que tener una visión profesional del ente hay que

más transparente y no salió adelante nosotros fuimos el único grupo que voto en contra de ese ere en el consejo de administración con lo cual es verdad muchos de los temas yo comprendo que ustedes acaban de llegar pero esos temas ya se han tratado aquí y que yo

con usted porque este grupo lo lleva reclamando desde hace tiempo ahora también le digo podemos poner un plazo pero de lo que se trata es que si queremos hacer una ponencia participativa que nosotros queremos que sea una ponencia participativa

todos los profesionales que sean posibles traer toda la documentación que sea posible traer otros modelos

que no estoy diciendo que nos pase como la legislatura anterior que llegamos

señora oregi usted habla de los resultados fructíferos que ha tenido e i te be hombre desde luego

para el gobierno vasco desde luego que ha sido fructífero porque si hubiera tenido que pagar de su propio bolsillo muchas de las campañas que se han realizado en e i te be desde luego le hubiera costado mucho con lo cual fructífero muchísimo yo

y lo que es información y como en muchas ocasiones

propaganda y no información por eso

incluso los adeptos acaban rechazando e i te be y tenemos las audiencias que tenemos por eso yo creo que hay que reformularlo tiene que ser un servicio público de calidad

todos los vascos y la pluralidad de las sensibilidades que en euskadi existan se sienta representada y no maltrata como en muchas ocasiones que ahora no me voy a referir pero que ejemplos tuvimos

bueno a empezar dirigiéndome a la señora romero con lo que ha hecho yo creo que quieren seguir repensando nosotros queremos que empiecen a hacerse propuestas

no queremos comprensión y empatía solamente queremos hechos y nos gustaría ya que veo que estamos en la misma onda

venga a esta cámara nuestra proposición de ley pues

señora oregi me ha parecido oír ciudadanos y ciudadanas como se diría ahora no es una cuestión de moda es una cuestión de necesidad y de justicia de verdad

que además de los llamamientos al consenso y las declaraciones generales de buenas intenciones quizá el gobierno debería hacer un ejercicio de autocrítica sobre la

reprobada por el parlamento algo que por cierto también debería explicarnos el partido socialista que fue uno de los partidos que reprobó su gestión una autocrítica sobre un modelo que a nosotras no nos gusta que fracasa estrepitosamente según las reglas del juego que han aceptado clonar a las cadenas generalistas privadas formadas en audiovisuales un modelo fracasado décimos a la vista

del desinterés de la ciudadanía hacía su televisión pública a la que nosotros amamos a la vista del descontento del sector audiovisual y cultural hacía un ente

es obvio que con este balance de resultados la señora iturbe no está en condiciones de defender ningún éxito en su gestión sino más bien todo lo contrario

también debiera hacer una reflexión sobre el hecho de haber tenido que pagar una multa millónaria para regularizar la situación de los falsos autónomos esos profesionales que se tuvo incumpliendo la ley y también una más sobre los llamados gestores personales

finalmente una autocrítica no vendría no vendría mal

no hay nada que definir se trata simplemente de ponerla en práctica en caso de no hacerlo se debería explicar a la ciudadanía repito porque se destinaron sesenta mil euros para el diseño

nosotras no vamos a permitirlo esta muy bien la transacción realizada por el pp pero

estamos de acuerdo por supuesto con cumplir lo que estipula la ley pero décimos con claridad lo que ya hemos dicho que el estudio se haga en función del diseño de la metodología de la upv no nos vamos a cansar de decirlo porque de lo contrario además del despilfarro del dinero público que supondría ignorarlo volveríamos a partir de cero algo que parece que es de interés de algunos de los grupos de esta cámara y del gobierno

organización y financiación nosotras tenemos claro que la participación ciudadana es un requisito indispensable imprescindible para afrontar esta reforma

al margen de sus destinatarias pero no basta con hacer llamamientos a la participación sin concretar el cómo y el cuándo se lo volvemos a decir

que nos indican precisamente como hacer un proceso participativo y con qué herramientas se debe hacer

hablar de buscar un consenso sin aceptar ninguna de nuestras propuestas francamente nos parece una tomadura de pelo agradecemos bueno pues al final que nuestra posición

esta me gustaría decirles que además de los llamamientos al consenso las declaraciones generales

me acabo de liar y ya hemos dicho que es una reforma que llega tarde y además de ello hay un diagnóstico compartido

en asumir nuestra responsabilidad y comprometernos a tener una propuesta concreta y consensuada en año y medio

a qué se han dedicado ustedes todo este tiempo en el que hablaban de sentar las bases de debate mientras no hacían absolutamente nada si ustedes le llaman consenso a que participemos de una estrategia de dilación y a que renunciemos a nuestro compromiso con la ciudadanía

de una radiotelevisión pública que actualice su modelo y que cumpla eficazmente su misión de servicio público

apoyo a la cultura vasca y acción eficaz en favor del euskera lo hemos hecho presentando una propuesta de ley con medidas específicas les volvemos a invitar a que las debatamos en este pleno en próximas fechas

señora arana es que hay cosa que me sorprende porque ahora todo es el estudio de la upv y el plazo

el documento de la upv porque no lo puso ni el plazo porque no le interesaba

porque sabía que existía porque lo había pactado con nosotros ahora lo importante es el documento de la upv que nosotros seguimos defendiendo y lo hemos puesto como base

en la transaccional que también se ha ofrecido y cuando hemos hablado de fijar después del plan de trabajo un calendario estricto para abordar

o sea no sé qué yo le entiendo que tuviera tal inquietud por la upv proceso participativo que no lo puso en su enmienda pero no se preocupe porque la transacción que va a ser aprobada gracias a los grupos que han aceptado pactar con

que ha sido el partido popular sí será posible gracias a nosotros se va a tener en cuenta

y vamos a tener un ritmo de trabajo ágil le vuelvo a decir que comparto que va a haber una modificación porque desde el momento en que tú le das la vuelta de arriba abajo va a tener que haber una nueva ley de e i te be

como la de comunicación audiovisual no tenga la mayor duda si en eso lo compartimos entonces no vamos poner el foco donde estamos en posturas diferentes

es el consenso para atender a e i te be y a sus trabajadores y trabajadoras y lo que queramos es otra vez poner fuego

yo no voy a entrar en eso insisto está muy preocupada por el informe la upv que no estaba en la enmienda ya se lo hemos recogido será la base de la ponencia está preocupada por los plazos estaremos atentas para fijarlos no se preocupe en eso tendrá usted una compañera de trabajo

leal porque lo que me interesa es lo que defendí hace dos años

con un documento vago no que se lo voy a hacer pasar porque como tiene muchas propuestas concretas le voy a mandar el link y así puede ver todas las propuestas concretas

porque cuando las cosas las hacemos mal tenemos capacidad de hacer autocrítica yo la primera

intentado no sé si lo mejor pero hemos intentado hacerlas bien también hay que decirlo entonces

que comparte muchas de las propuestas o que está dispuesta a estudiar muchas de las propuestas que hacemos y lo mismo a eh bildu no entiendo cuál es nuestra diferencia en este caso no entiendo nuestra diferencia yo no soy profesional de e i te be no tengo la doble visión

gran medida el acuerdo que hoy vamos a someter a votación como lo estuvieron también en la anterior legislatura porque a nosotros

y cuándo no ha estado y eh bildu estuvo en ese trabajo como estuvimos nosotros de pedir una reforma integral y pedirla de esa manera

abrimos las puertas no las cerramos al consenso a pesar de todo hay un espacio tremendo y la gente está esperando respuestas políticas para lo que le corresponde

pero solo si nosotros y nosotras hacemos después del trabajo de la ponencia una ley de reforma acompañado o no de una ley de comunicación audiovisual estaremos haciendo nuestro trabajo mientras sigamos incendiando
en vez de tomar decisiones pues estaremos frustrando una vez más a la gente gracias eskerrik asko romero

hitz egiten ikusita y siento orgullo de etb señora llanos no me refería cuando digo que

hablaba de treinta y cinco años de historia y me sumo a muchos

que ha hecho la señora agirre desde eh bildu desde el corazón de los que conocimos el arranque

yo en mi caso como espectadora en algún lugar al que llegaba la señal y era una gran ilusión para nosotros siento ese orgullo como le digo

que hacen todos los días posible etb y que todos los días estemos escuchando la radio viendo la televisión

y creo que en este punto hay algo que debemos de tener en cuenta y que debemos de ser cautelosos creo que tenemos que ser capaces de separar el debate del día a día

por el bien de todos creo que es importante que marquemos una diferencia entre el debate que tengamos en la ponencia un debate que debe marcar esa reforma integral un debate que nos debe llevar a un análisis de todas las cuestiones desde el marco legal señora arana desde la gobernanza desde la mejora de las diferentes cuestiones desde la eficiencia de contenidos etcétera

no podemos estar poniendo en cuestión todos los días la profesionalidad la capacidad de trabajo el trabajo de los profesionales que todos los días salen en antena todos los días salen en la pantalla y tiene que llevar adelante su trabajo de una manera

lo más sosegada posible como decía antes señora arana es difícil

cuando prácticamente el acuerdo o la transacción que hemos acordado entre tres grupos es prácticamente lo mismo que han venido ustedes defendiendo

ustedes querían que hoy en el pleno se marcase un espacio temporal un marco de meses que empezó en una cifra siguió en otra y podría haber evolucionado a otra cuando no tenemos datos suficientes y necesarios

cuál debe de ser ese espacio de tiempo cuando todavía no tenemos una metodología aprobada es cierto que tenemos una metodología puesta encima de la mesa por la upv pero que en ningún momento porque terminó la legislatura fue presentada escuchada analizada y dada por buena por los grupos de esta cámara creo que eso es una herramienta fundamental si ponemos en marcha un espacio de trabajo sea en el ámbito que sea debemos de establecer una metodología y junto con la metodología

un calendario de actuaciones pero es que eso lo tenemos que hacer

somos muchas fuerzas políticas y debemos hacerlo de acuerdo entre todos y no como usted cree que tenemos que hacerlo su opinión está bien pero también hay otras

si me permiten la licencia esta semana hemos celebrado algún miembro de esta cámara en las redes sociales lo ha resaltado el día mundial de la radio

hizo un manifiesto como tiene por costumbre hacer y es muy bonito les leo tres frasecitas solo porque cambio radio por e i te be y me quedo con su discurso

en esta época de turbulencias la radio constituye una plataforma sólida para unir a las comunidades es una fuerza al servicio de los derechos humanos y la dignidad

para ello es necesario renovar el compromiso de todos con la radio renovemos todos nuestro compromiso con e i te be eskerrik asko

no cuestionamos de ninguna manera su amor por e i te be puede estar usted tranquila lo que sí nos sorprende un poquito es cómo

y cuáles van a ser los plazos para aplicar esa metodología porque nos hace temer que esta vaya a ser otra legislatura perdida eso es lo que nos preocupa

y nosotras tampoco comprendemos bien por qué el partido socialista que hasta hace unos meses defendía la creación de una comisión especial esa la de las puertas abiertas y ahora sin embargo defiendan la creación de una ponencia sin más hemos intentado llegar a un consenso hasta el último minuto

y los plazos no ha podido ser y es por eso que nos vamos a abstener uste dugu